euskadi es una de las sociedades más longevas del mundo han contribuido a ello entre otros los avances médicos y el trabajo de impulso de hábitos de vida saludables en los que vienen trabajando desde hace años

y ocupan del colectivo de personas mayores creando mecanismos para hacer de nuestros barrios municipios y ciudades entornos en los que se sientan cómodas hemos tenido conocimiento del impulso dado a la red

basado en el programa de la organización mundial de la salud para entornos adaptados a las personas mayores por ello

cuáles son las características concretas de la red euskadi lagunkoia sustraietatik asimismo queremos qué aportan a la mejora de la calidad de vida de nuestras personas mayores y cómo benefician y facilitan directamente el día a día de este colectivo

el máximo tiempo posible y en las mejores condiciones en su entorno cotidiano y más próximo entendemos fundamental la colaboración entre todos los niveles institucionales de euskadi a fin de poder crear espacios más amables para este colectivo es un trabajo conjunto y constante a implementar a lo largo de los años

supone y supondrá un valor añadido en la gestión de la amigabilidad por parte de todos los agentes implicados lehen fase honetan zenbat

compartimos la necesidad de construir ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores debiendo contar con ellas para proceder a dicha planificación

de los países de nuestro entorno que vengan trabajando en esta línea

herri eta hirietan eroso egon daitezen ahaleginak egin ditugu la amigabilidad ha ganado peso y desde el gobierno vasco además hemos apostado por una estrategia de envejecimiento activo basado en tres pilares

con un nuevo modelo de gobernanza en el que las personas mayores sean protagonistas y participen en la toma de decisiones la anticipación y prevención para envejecer mejor

en este marco y basándonos en el programa de la organización mundial de la salud para entornos adaptados a las personas mayores en euskadi somos impulsores de la red euskadi lagunkoia

cuenta en la actualidad con cuatrocientos ciudades y comunidades de treinta y siete países que están trabajando en esta línea pero en nuestro entorno europeo estamos inmersos en la denominada

que supone vivir más años en mejores condiciones hauek dira euskadiko lagunkoiaren helburuak primero

y ciudades de euskadi como generadoras de bienestar segundo crear y fomentar procesos de participación comunitaria hirugarrena ekipen lagunkoi

por un lado quisiera destacar la iniciativa que hemos desarrollado junto con el área comercio

de la puesta en marcha del establecimiento amigable el programa pretende dar facilidades a los establecimientos que deseen convertirse en más amigables

son pautas y recomendaciones sencillas para prestar un servicio de calidad a todas las personas y en especial a las personas mayores

y solicitada por la comunidad valenciana como referencia básica para la elaboración de su guía sobre temática otra iniciativa que quisiera destacar es la del legado que ha sido seleccionada por la oms entre las nueve mejores prácticas a nivel mundial para combatir el edadismo y la estigmatización de las personas de más edad

como iniciativa que favorece una imagen positiva sobre el envejecimiento mediante esta iniciativa

vasco a través de unos vídeos con testimonios de personas mayores euskadi lagunkoiak egindako diagnostikoaren arabera ikusi zen etxebizitza zela esku hartzeko ardatz nagusienetako bat por este motivo durante este año

una guía para una vivienda amigable en la que se van a reconocer algunos consejos para adaptar el hogar a las necesidades de las personas que envejecen además de ofrecer información sobre las posibilidades de ayudas y recursos disponibles y demostrar otras alternativas de vivienda cuando se torna complicado mantenerse en el hogar

iniciativa ejemplar y así en edimburgo en el marco del congreso de salud y cuidados euskadi lagunkoia ha sido seleccionada como buena práctica

estuvo presente en las jornadas sobre envejecimiento activo organizadas por la onu en lisboa del veinte a veintidós de septiembre eta sare

señora presidenta señorías señor lehendakari buenos días ondo da autoestimua goian edukitzea

betikoekin aquí con los del ciento cincuenta y cinco

en relación al grado de desigualdad señora agirre en euskadi tres datos estadísticos tasa de riesgo de pobreza en euskadi

el diecisiete por ciento gasto en protección social por habitante

índice gini que mide el grado de desigualdad euskadi se sitúa entre los diez primeros países europeos en igualdad y equilibrio social beraz

legebiltzarkideok lehendakari jauna qué ha llevado al gobierno vasco a pasar de defender

que había margen para incrementar la presión fiscal en el impuesto de sociedades a rebajar

simplemente le diré que la fiscalidad hay que analizarla en su integridad usted dice que el tipo nominal se reduce en cuatro puntos y tendrá que admitir por contra

que se eliminan deducciones tendrá que admitir que el plan de reactivación económica y las nuevas medidas permiten que más empresas coticen y con mejores resultados tendrá que admitir y reconocer las nuevas medidas anti elusión que se han aprobado eskerrik asko

el acuerdo pero se acuerda usted de cuando decía

hacía falta una reforma integral o que decía que la presión fiscal a las empresas era muy baja o de cuando respondía a la patronal que de rebajas nada se acuerda cuando se mostraba usted en desacuerdo con el señor rementeria cuando unas semanas antes firmó usted

que no rebajaba el tipo nominal del impuesto de sociedades durante unos días fue incluso una línea roja

a mí me gustaría saber cómo este gobierno puede pasar

a firmar quince días después otro con el partido popular en el sentido absolutamente contrario que aplaude a rabiar esta misma patronal hacen ustedes

tengo otros desde luego este gobierno siempre está dispuesto a cambiar sus principios para contentar a la patronal porque al contrario de lo que ha dicho algún miembro de esta cámara para pactar lo importante no son los prejuicios si no los principios permítame señor urkullu no ya que dude sino que niegue

vaya a reactivar la economía o a crear empleo según los datos del propio señor azpiazu los de su gobierno ya tenemos una presión

esta nuestra economía mejor que la europea es evidente que no así que qué argumento tiene para afirmar

va a ayudar a nuestra economía o va a ayudar a la creación de empleo en tanto en cuanto aquellas empresas que siempre defendemos las pequeñas y medianas no ven ningún tipo de beneficio en esta

porque esta reforma fiscal no está pensada para crear empleo está pensada para que aquellos que más tienen paguen menos impuestos

habla usted de estabilidad del país señor urkullu de estabilidad institucional

tener de socio al pp es de todo menos estabilidad institucional

la mano del partido popular lo único que se hace más estable son más políticas regresivas y más políticas antisociales pero no se equivoquen

solo para decir que todo va mal elkarrekin podemos no se va a quedar de brazos cruzados

es solicitar a la mesa del parlamento vasco que se celebre un pleno monográfico sobre fiscalidad en tres meses

y que esperamos y nos gustaría contar con el partido socialista de euskadi para apoyar que no creemos además que tenga ningún problema en apoyarla ya que venía literalmente en su programa electoral con el que se presentaba hace un año a las autonómicas eso sí esta es la primera medida

este parlamento no se va a quedar mudo ante tamaño ataque a la justicia social

van a tener que elegir ustedes con la gente con los trabajadores y trabajadoras o con la patronal

para tener credibilidad agradecería que el espíritu y el sentido de lo que

luego sucede o lo que se dice ante los medios de comunicación sea por situaciones internas que se llevan en los partidos o sea por cualquier otra circunstancia en cualquier caso el gobierno siempre ha defendido la misma postura primero evaluar la reforma fiscal anterior lo hemos hecho y segundo si fuese necesario introducir modificaciones fiscales con un amplio consenso en las juntas generales de los tres territorios también lo hemos conseguido

para negar algo que además ha reconocido que desconoce en todo caso además el gobierno siempre ha primado los mismos objetivos para estas modificaciones garantizar la suficiencia financiera para la prestación

al crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo y estos dos objetivos se cumplen con las modificaciones fiscales acordadas y en cuanto a las modificaciones del impuesto de sociedades no sea usted reduccionista la recaudación de este impuesto depende de seis factores

deducciones número de empresas cotizantes resultados de las empresas control de la elusión

reitero la fiscalidad hay que analizarla en su integridad mire el conjunto de estas medidas va a permitir garantizar los dos objetivos que perseguimos los dos garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y favorecer la competitividad de la economía real por lo tanto positivo y positivo es positivo

insisto en la mirada integral señor martínez la recaudación del impuesto de sociedades no depende del tipo nominal como usted lo basa este es solo uno de seis factores

la valoración es positiva porque podemos contar con más inversión más empresas y más competitivas que cotizan y aportan más y es cierto sí que el mundo de la empresa había solicitado una reducción del tipo nominal

no había solicitado la eliminación de determinadas deducciones y también se han aprobado señor martínez beraz lortu dugun akordioa zabala da

ona da eta positiboa izango da gure oraingo eta etorkizuneko ongizatearentzako y reitero también nuevamente usted dice que el tipo nominal se reduce en cuatro puntos y tendrá que admitir insisto que el tipo

a la vista del acuerdo que se eliminan deducciones tendrá que admitir también que el plan de reactivación económica y las nuevas medidas permiten que más empresas coticen y con mejores resultados y estoy seguro de que tendrá que reconocer también

anti elusión que se han aprobado serán positivas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

señorías buenos días a todos y a todas señora consejera la perspectiva de géneros según la comisión europea significa la toma en consideración

se trata de incorporar de forma sistemática en las políticas y planes y en las actuaciones y acciones

y promover la igualdad entre unos y otros el contexto de la prevención de riesgos laborales no es ajeno a esta necesidad existe

en las actividades preventivas y de vigilancia de la salud es un hecho detectado en las sucesivas encuestas nacionales de condiciones de trabajo las diferencias en la localización y tipo de patologías

relacionadas con el trabajo sobre esta realidad diferentes instancias a nivel estatal europeo han llamado la atención sobre los diferentes riesgos a los que se encuentran sometidos trabajadores y trabajadoras las condiciones laborales la segregación de tareas o simplemente las diferencias biológicas es indudable

más relevante son las condiciones laborales en este marco hay que referirse a que la mujer es la que reúne

que la brecha salarial existe mención especial merece sexual y moral una manifestación más de la violencia contra la mujer y que en muchas ocasiones está invisibilizada sin apenas estadísticas lo que hace

por otra parte para hacer una evaluación correcta de los riesgos a los que está sometido cada persona

que hay que tener en cuenta las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo pero que se debe añadir las no remuneradas y que se desarrollan fuera del ámbito laboral

bien sea la de promover la igualdad de hombres y mujeres con la ley tres barra dos mil siete de veintidós de marzo como la ley de protección contra la violencia de género

hacen hincapié en la necesidad de abordar estos temas dado

en que se desarrolla el trabajo y más concretamente en lo referente a la prevención de riesgos laborales en euskadi también la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero

obliga a las administraciones públicas vascas a que en el ámbito de sus competencias promuevan las condiciones para conseguir la igualdad efectiva

haciendo mención expresa a las condiciones de trabajo y a la prevención de la salud señora consejera conocemos la preocupación del departamento de trabajo y justicia especialmente del organismo autónomo de él dependiente osalan por este asunto dentro de las actividades que periódicamente organiza osalan el pasado catorce celebraron unas jornadas sobre la integración de prevención de género

con una nutrida representación participación

por eso le pregunto señora consejera qué otras iniciativas han llevado a cabo o tienen previsto realizar para incorporar la perspectiva de género en la prevención

efectivamente señora sánchez en la jornada del pasado catorce de noviembre a la que usted se ha referido

dos de los últimos trabajos que ha realizado osalan desde la perspectiva de género uno es la guía pautas para la integración de la perspectiva de género

que explica cómo entiende osalan qué debería que explica cómo entiende osalan qué debería incorporarse el enfoque de género en la gestión preventiva de las empresas utilizando como herramienta el plan de prevención cumplido el objetivo de terminar y difundir la guía en dos mil diecisiete se trabajará en un futuro en el seguimiento de su implantación en las empresas y organizaciones

de accidentabilidad laboral y enfermedades profesionales que tiene por objeto realizar un análisis desde la perspectiva de género de las condiciones laborales

son dos documentos que tuvieron una gran acogida entre los participantes en aquella jornada la mayoría de ellos de la prevención en diferentes empresas hoy mismo he remitido al letrado mayor y a la presidenta de la cámara copia de ellos para que sean distribuidos entre todos

estos trabajos están enmarcados en un contexto más global que se define en los sucesivos planes de gestión anuales de osalan en la estrategia vasca para la seguridad y salud en el trabajo dos mil quince dos mil veinte

para lograr una mayor eficacia de nuestras iniciativas se ha buscado la colaboración con emakunde fruto de esa relación a finales de dos mil quince se firmó un convenio entre los dos organismos

se ha configurado un grupo de trabajo conjunto para el desarrollo y seguimiento del mismo como resultado de esa colaboración ha surgido diferentes acciones como son formación mutua

para el personal de osalan y a su vez osalan ha impartido al personal de emakunde una sesión formativa sobre funciones del organismo y conceptos básicos de prevención y esta labor formativa se ha extendido al personal técnico y sanitario de las organizaciones preventivas otra acción es la divulgación osalan ha organizado las jornadas de prevención de riesgos laborales con enfoque de género en dos mil quince y dos mil diecisiete en el marco del foro de igualdad de emakunde atención a las consultas de ciudadanía se han mantenido reuniones para elaborar un protocolo de atención

revisión de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y sexista

que hiciera aportaciones sobre un borrador de protocolo y a partir de ahí

lo que se prevé acometer en dos mil dieciocho otra de las labores emprendidas ha sido

y sensibilización para ello se ha elaborado un tríptico sobre salud reproductiva y se ha organizado un evento divulgativo cada año asimismo se ha dado mayor visibilidad al tema situando al género como una de las áreas de actuación en la nueva web corporativa del organismo

abordando osalan así como sus resultados resumiendo señora sánchez en osalan existe una conciencia clara de la importancia de incorporar la perspectiva de género en sus actividades

para ello nos remitimos a las normas más progresistas y colaboramos con las instituciones responsables muchas gracias por su atención eskerrik asko

lehendakari consejeros consejeras señorías cuando alguien recibe dinero público sobre bases falsas algo falla lehendakari igual me dice que son otras instituciones pero usted es el responsable del plan de paz que es un plan para todas las administraciones es

el departamento del gobierno que alberga la secretaría general de derechos humanos y convivencia y en ese ámbito aprueba el plan de convivencia derechos humanos hasta el dos mil veinte en el que se habla de la coordinación de las

la diputación foral de álava el ayuntamiento de vitoria se han pagado recientemente campañas propagandísticas de etxerat en sus folletos se habla

como exiliados y deportados políticos aquí está el documento como responsable máximo del plan de convivencia cómo valora

como lehendakari respondo en este parlamento y específicamente en esta sesión de control sobre las subvenciones y actuaciones que comprometen al gobierno vasco lo propio lo lógico y razonable es que usted si no lo ha hecho ya y su partido si no lo han hecho ya dirijan esta pregunta a las juntas generales o al pleno del ayuntamiento correspondiente y si a mí me dirige la pregunta sobre lo que es la coordinación mire la coordinación a la que usted alude

no implica responsabilidad compartida en la concesión de subvenciones y ayudas por parte de otras instituciones y quiero recordarle que etxerat es una asociación legal

las subvenciones vinculadas a la actividad que desarrolla de la misma forma usted tiene pleno derecho a recurrir estas subvenciones si considera que se les ha dado un uso inadecuado y si tiene previsto hacerlo señor barrio le recuerdo que ha habido ya

y por el ayuntamiento de vitoria gasteiz estos recursos fueron presentados por la delegación del gobierno e insisto

gracias lehendakari vamos a ver yo le hablo de una campaña falsa

no hay deportados y exiliados políticos y hay una campaña que es falsa usted es el coordinador de un objetivo de encuentro social que es el plan de convivencia opción por la empatía dice usted poca empatía cuando hay campañas falsas además que insultan a las víctimas del terrorismo cultura de la convivencia dice el plan y sobre falsedades no se

el plan dice mesa de trabajo con diputaciones forales y eudel que tendrá como objetivo poner en común las políticas relativas a la agenda de la convivencia

coordinar una mesa de trabajo con diputaciones y ayuntamientos gogora usted preside gogora el instituto de la convivencia de la memoria y están los tres diputados generales y usted y eudel y eso no son los valores

llamando presos políticos a los asesinos no son los valores de la convivencia y de la memoria

si se permiten falsedades e insultos a las víctimas no creo que se refuerce ese objetivo del plan en varias ocasiones habla los folletos pagados por las instituciones que su partido controla de presos políticos deportados exiliados políticos es decir

asesino mikel karrera sarobe cadena perpetúa en francia es un

de fernando múgica entre otras víctimas es un preso político

y asesino del comando

huido de la justicia es un exiliado político es posible que no le gusten estas preguntas pero es que hay que valorar las cosas que hacen nuestras instituciones y que usted coordina

subvenciones a etxerat espero que controle que las campañas que se subvencionan sean legales estén basadas en criterios de convivencia es decir podemos

señor lehendakari pero sepa usted que nunca vamos a estar de acuerdo con políticas públicas que tergiversen la realidad

o que maltraten a las víctimas del terrorismo y la campaña de etxerat es un insulto a las víctimas del terrorismo y busca blanquear a eta y a sus miembros

que engloba a esas instituciones financiadoras muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor barrio le he indicado el camino que puede seguir usted

ni me gusta ni me disgusta ni me deja de gustar las preguntas y las interpelaciones que a mí se me hagan las admito las admito en todo caso

respetando los ámbitos de decisión del resto de instituciones señor barrio y sí le puedo decir que el gobierno vasco y yo personalmente como lehendakari no

sí le puedo decir también que el gobierno vasco también la diputación foral de araba y el ayuntamiento de vitoria gasteiz en lo que es la coordinación del plan

hemos dado sobrada muestra con palabras y hechos del respeto que nos merecen las víctimas del terrorismo y de nuestro radical rechazo a la violencia de eta y sí le puedo decir también señor barrio en relación a lo que usted ha dicho antes en su primera intervención sobre falsedades que independientemente

no comparte la política penitenciaria que desarrolla el gobierno español y de hecho el plan de convivencia y derechos humanos realiza propuestas orientadas a su modificación

y de la sociedad vasca compartimos la necesidad de poner fin a la política de alejamiento de las personas presas alejamiento

cambiar esta política significaría como acaba de evidenciar un informe de la universidad de deusto poner fin a un sufrimiento que impacta en las familias de las personas presas a las que representa etxerat y probablemente

neurgailu bat el índice de precios al trabajo inek ere egiten du

es evidente que durante estos últimos años se ha dado una contención salarial

el consejo de relaciones laborales de euskadi se ha ocupado recientemente del tema salarial en su último informe trimestral

cómo efectivamente en el periodo dos mil ocho dos mil dieciséis el coste laboral anual en euskadi había aumentado tan solo un cuatro coma siete por ciento en comparación con el cinco coma dos por ciento del estado

un nueve por ciento lo que suponía una pérdida de poder adquisitivo de algo más de cuatro puntos

de los convenios vigentes fueron superiores al dos por ciento anual

el incremento fue inferior al uno por ciento la llamada deflación salarial ha sido sin duda una de las claves del modelo de ajuste a la crisis que ha sido la economía vasca al igual que la economía española con la que comparte el marco regulatorio en la actualidad sin embargo la economía vasca presenta un crecimiento sólido con creación de empleo y a la vez

mayor que el de la economía española que nos da margen para subir los salarios de una manera no inflacionaria gaur egun halaber euskal ekonomia hazkunde trinko bat ezagutzen du

igo barik la recuperación de nuestra economía es una realidad y cada vez está más cercano el momento en el que el banco central europeo sacará

los analistas estiman que el banco central subirá los tipos a finales de este año o a principios del próximo no se esperan nuevos movimientos a corto plazo salvo que la economía

y se abrirá la puerta a un nuevo ciclo en el que es necesario que las familias tengan poder adquisitivo para no verse atrapadas por la subida de los precios

por lo tanto ante un escenario de normalización de la política monetaria el consumo va a precisar de una subida salarial una subida de salarios que vacunaría la economía vasca contra la ralentización del consumo porque sin el empuje del poder adquisitivo de los trabajadores el producto interior bruto

de la economía volvería a su punto anterior

de equidad teniendo en cuenta que la distribución de la renta ha empeorado con la crisis sobre todo

más bajos pero también razones económicas por la sostenibilidad del modelo de crecimiento que los vientos de cola de la política monetaria los precios de la energía y el tipo de cambio dejen de jugar a favor y también por la preocupación de que la expansión del empleo fuera reduciéndose como he dicho anteriormente otras voces más autorizadas que la mía se han sumado a esta idea desde el consejero delegado del banco sabadell

mario draghi que ha pedido a los agentes sociales que den prioridad a las subidas salariales porque europa ha dicho necesita incrementos de sueldos

dituelako en efecto ante la constatación de que la inflación no termina de recuperarse a pesar de la política monetaria desarrollada hasta el momento

las políticas de rentas unas subidas salariales nada fáciles de imponer porque dependen de la evolución de la productividad y cuya fijación corresponde a los agentes

a cabo una subida salarial sin menoscabo de la posición competitiva de la economía vasca es decir sin aumento de los costes laborales unitarios porque la productividad está creciendo

los costes laborales por hora en euskadi han crecido un diez por ciento desde el año dos mil ocho menos que en el entorno europeo

y eso es positivo se ha recuperado la competitividad relativa además teniendo en cuenta la evolución de la productividad los costes laborales unitarios

a quince y los países avanzados para el conjunto de la economía

la mejoría relativa ha sido muy clara porque se han reducido un quince por ciento respecto al dos mil ocho cuando en europa han crecido un cinco por ciento

pero me ha parecido importante ilustrar cuál es nuestra verdadera situación entiendo que en estos momentos es posible y conveniente una mejora salaria sin caer en los errores de la primera etapa de la unión monetaria en las que perdidos competitividad a raudales por tener incrementos de precios

sin que por ello mejorará la situación del trabajo asalariado

sociales de dos mil dieciséis ya se advertía una mejora clara en las rentas más bajas y eso es muy positivo pero las recientes estadísticas coyunturales

despegar de ahí que mi advertencia siga teniendo vigencia a

han colaborado en la recuperación de nuestra economía asumiendo el esfuerzo y sacrificio del recorte de sus nominas en un momento en que la situación mejora

margen para que los sueldos crezcan y evitar que la economía vasca de un paso atrás

el aumento del empleo y de los salarios son los factores determinantes del consumo de la demanda y del crecimiento económico ahora bien en todo caso la regulación de los salarios depende fundamentalmente de la negociación colectiva

el que las subidas tengan ese largo alcance es evidente

de estos últimos años han provocado un cambio sustancial en el modelo de relaciones laborales pero en definitiva la negociación colectiva es un asunto

son dichos agentes los responsables de que la negociación colectiva se lleve a cabo y tenga sus frutos

donde se tienen que decidir las subidas salariales tal y como se pronunció en el parlamento vasco el pasado veinticinco de mayo

se sustenta en la autonomía de las partes los gobiernos como es el caso del gobierno vasco

desde el gobierno solo nos compete facilitar lugares de encuentro y diálogo permanente insistir y favorecer en que se abran las vías de concertación para lograr dicho objetivo y para el desbloque de la negociación colectiva tal y como así también se pronunció el parlamento vasco un punto de partida primordial

sobre la estructura de negociación colectiva de diecisiete de enero de dos mil diecisiete al igual que en el pleno de esta cámara yo creo que dicho acuerdo

de contenido mediante el cierre de los oportunos acuerdos entre los protagonistas del mismo es decir entre las organizaciones sindicales y empresariales eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari me sorprende y me apena que no haya respondido usted de forma directa a esta interpelación que a usted se le dirigía todo el mundo

está hablando de la problemática de los salarios y yo creo que la ciudadanía de esta comunidad que usted preside se merecía conocer su opinión más cuando es directamente interpelado

la totalidad de las personas de este país y es un tema que está mal y es una pena que usted no haya venido aquí a dar su posición como lehendakari presidente de este gobierno y máximo líder político de esta comunidad sobre una problemática central que está yendo mal me gustaría

por eso entre los retos estratégicos de su gobierno no aparece ninguna mención a los salarios ni a la recuperación de poder adquisitivo

por eso en su acuerdo de gobierno prácticamente con el partido socialista la palabra precariedad y las problemáticas relacionadas con el mercado del trabajo prácticamente ni se mencionan y además de apenarme

que haya sido el señor azpiazu el que haya venido aquí a decir que está a favor de una subida de salarios

como ha tenido con la reforma laboral quizás confebask venga a imponernos ahora una regresión generalizada de salarios en todo caso no sé por qué si usted

responder no han sido las consejeras de trabajo o de empleo que tienen más relación con la materia que está directamente relacionada también

y por qué ha sido el consejero azpiazu que parece tener muy buena voluntad pero muy poca capacidad de incidencia en las políticas económicas de este país

los salarios no están paralizados porque no haya negociación colectiva la patronal ha paralizado la negociación colectiva para que no suban los salarios

sí altera el producto porque determina dónde están las responsabilidades antes se jactaba de su balance de la legislatura de que el setenta y cinco por ciento de trabajadores y trabajadoras tienen un trabajo

a jornada completa hombre hombre pues es que no la jornada completa no entonces qué ha dicho indefinido

está en la parcialidad y yo tengo otros datos el treinta y dos por ciento está en la parcialidad según el consejo de relaciones laborales el sesenta y cinco por ciento únicamente tiene un trabajo fijo y en cuanto a jornada completa y parcial el setenta y cinco por ciento tiene completa y el veinticinco parcial es decir el veinticinco por ciento de trabajadores y trabajadoras jornada parcial y una tercera parte

temporal el noventa y tres por ciento de los contratos que se firman son contratos temporales solo está en vigor el treinta y siete coma cinco por ciento de los convenios

la subida salarial de los nuevos convenios es de media de uno coma sesenta y dos por ciento es decir ni a través de la negociación colectiva porque a veces se dice es que hay ciertos sindicatos que no quieren negociar y otros sí con ellos sí se firman convenios la media de los convenios es uno coma sesenta y dos la media de los convenios a día de hoy creciendo al tres por ciento y con el pib del dos mil ocho significa que un mileurista se embolsaría dieciséis euros mensuales más al mes la media de los convenios a día de hoy de los que se firman significa

poder adquisitivo y esa es la realidad y yo creo que es una realidad que merece la pena que el lehendakari la valore y que el gobierno la valore porque además es una realidad que se está cebando

bastante menos que los hombres que existe un importantísima brecha salarial y también en los más pobres porque la bajada de poder adquisitivo no está siendo uniforme y si analizamos la estructura de los salarios por deciles

sucesivamente vemos que la bajada y la pérdida de poder adquisitivo está concentrada precisamente deciles es decir en la mitad que menos cobra es decir todavía están teniendo mayores dificultades las personas que previamente

y por tanto entendemos que esto urge a una política activa yo no sé me gustaría que

con la misma beligerancia que se enfrenta a ciertos sindicatos dijera ciertas cosas a la patronal

subir los salarios que esos empresarios que piden reconocimiento social porque saben que todavía les falta reconocimiento social se les exigiera que actuaran de forma responsable

con la mayoría trabajadora que también contribuye hacerlo posible y además de forma determinante me gustaría otro empresariado y me gustaría un gobierno más asertivo

señor casanova no sé si debo darme por vetado para responderle a usted

de mercado nos guste o no y también es una democracia parlamentaria con lo cual yo creo que esto de imponer a los demás cuando no les corresponde

pero al menos sí le puedo decir que tanto unos como otros hemos sido coherentes con

el gobierno vasco ha establecido una clara prioridad en la recuperación salarial de los trabajadores del sector público siempre siempre dentro de las limitaciones presupuestarias y en el marco

hemos procedido a incrementar los salarios un uno por ciento en el año dos mil dieciséis y dos mil diecisiete

a este proyecto de presupuestos sabemos que se siguen y seguirán existiendo limitaciones pero no puede negarse ni nuestro compromiso en este ámbito incluso de forma unilateral ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales

no pueden no se pueden menospreciar y menos a la vista de lo que ocurre con la evolución de los incrementos en los convenios vigentes

y que ello no ayuda precisamente a conseguir el objetivo pero desde la responsabilidad que me compete por la marcha de la economía tengo que reiterar mi discurso de que la continuidad de nuestro crecimiento saldría altamente favorecida si hay un crecimiento más equilibrado de las diferentes rentas

de aquella recomendación está claro que una subida salarial no tiene por qué ser universal porque hay empresas en dificultades pero sí debe de darse en los casos que sea posible

pauta no evidentemente no tampoco quisiera entrar a cuantificar el porcentaje de subida como no lo he hecho en otras ocasiones pero sí quiero dejar claro

también responsables y tener claro cuánto les puede dar su empresa

al cierre por ejemplo sería una autentica irresponsabilidad

que estoy convencido de que la dinámica demográfica va a transformar en pocos años el mercado laboral

una restricción al crecimiento y que ello finalmente impactará en los salarios pero hoy por hoy el problema sigue siendo el estancamiento y el hecho de que ya

grandes desigualdades el gobierno y sus miembros en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades

señales al sector privado en esta misma dinámica debe encuadrarse la resolución aprobada como decía antes del parlamento vasco el veinticinco de mayo una resolución que iba dirigida a las dos partes concernidas en la negociación colectiva y les insta a las dos a la patronal

de las partes se critiquen las mismas por parecer demasiado liberales o demasiado timoratas pero eso no significa que no sean ajustadas es más estoy firmemente convencido
de que lo son y espero haber aportado evidencias suficientes con mi intervención eskerrik asko eskerrik asko

egun on guztioi lehendakari jauna el pasado veintiuno de noviembre el gobierno vasco entregó los premios joxe maría korta dos mil diecisiete a cuatro empresarios vascos esos premios son concedidos por el gobierno vasco a partir de la valoración de un jurado que en este dos mil diecisiete

representantes del gobierno vasco de las asociaciones empresariales confebask

nos habría gustado que en este reconocimiento se hubiera visto la paridad que todas defendemos en los discursos para los distintos ámbitos de la sociedad y más si cabe en aquellos espacios que todavía

reconocidas en este premio que entrega el propio gobierno vasco décimos preguntarles qué valoración hace el gobierno vasco

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora arana quiero comenzar por reconocer que comparto también su sensación asimismo como usted dice también

que tampoco yo pongo en duda la valía de los empresarios premiados

por las asociaciones empresariales corporaciones mercantiles o colegios profesionales

el jurado en el que sí en el que participa el gobierno vasco solo tiene capacidad de decisión sobre las propuestas que han sido presentadas

y ni el gobierno por lo tanto pueden presentar candidatos o candidatas a estos premios

dos de las cuatro personas premiadas fueron mujeres el año pasado este año sin embargo el jurado se ha encontrado

el objetivo de estos premios es reconocer toda una trayectoria vital a empresarios o empresarias según las bases cito textualmente una vida dedicada a la empresa estamos hablando por lo tanto en la mayoría de los casos de proyectos empresariales que surgieron a mediados del siglo pasado una época en la que habremos de reconocer

pero quiero reconocer y quiero remarcar una circunstancia muy significativa

pero también en la entrega de premios se ha constatado que en muchos casos quienes dan continuidad a estos proyectos aunque hayan sido los premiados quienes dan continuidad a estos proyectos hoy en día son mujeres estoy convencido por lo tanto de que el número de mujeres empresarias nominadas y premiadas

eskerrik asko decía usted que quienes están detrás son mujeres a las que queremos ver delante a las que queremos ver delante son a las mujeres y no a los hombres en euskadi señor lehendakari

y los hombres en el ámbito empresarial la asociación de empresarias y directivas de bizkaia

de la situación real de las mujeres en el mundo de la empresa hace apenas un año decían que euskadi está a la cola del estado español en provisionar puestos de mujeres directivas en sus consejos según la ley de igualdad las grandes empresas deberían tener un cuarenta por ciento de representación femenina en sus consejos de administración euskadi no lo está cumpliendo

mostraron la preocupación por la brecha salarial la violencia machista la paridad el techo de cristal los medios o los falsos mitos en la contratación de mujeres según ampea la cultura empresarial está basada en estereotipo masculino y frena la promoción de las mujeres en las empresas

las mujeres están preocupadas por la visibilidad de las mujeres empresarias y por ello están trabajando por el reconocimiento profesional este sería un buen hecho que se le reconozca profesionalmente

y que las mujeres estén más representadas las integrantes de aspegi piden también que no se ejerza el paternalismo con ellas

veces lleva a que no se les ofrezca un ascenso porque se da por hecho que las cargas familiares les van a impedir aceptarlo

a estas alturas no hace falta que entre en profundizar en la ley cuatro barra dos mil cinco del dieciocho

nuestra ley de igualdad establece una serie de competencias y funciones para promover y fortalecer la posición social económica y política de las mujeres en las que la administración de la comunidad autónoma tiene un rol fundamental nos gustaría que nos informe sobre la integración del tribunal que ha fallado los reconocimientos y si este cumple con el artículo veinte de la ley de igualdad

para terminar con esta invisibilidad manifiesta de las mujeres empresarias hace años que se entregan y hace años que no hay reconocimiento para las mujeres empresarias en los últimos nueve años en el dos mil nueve seis

dos mil diez seis hombres dos mil once cuatro hombres dos mil doce

aquí debieron de contactar con el cuarto poder a ver si encontraban mujeres en algún sitio y realmente reconocieron a dos mujeres y dos hombres dos mil diecisiete volvemos a las cifras de antes cuatro

y que tome ejemplo y que no participe en aquellos premios donde no son visibilizadas las mujeres y donde no son premiadas tómese en serio las políticas de igualdad

determinadas cuestiones ni lo que puedan ser las intervenciones tampoco del lehendakari diciendo o poniendo en mi boca lo que no he dicho señora arana permítame dirigirme a usted con el debido respeto

para decirle que lo que he dicho es que es cierto que la mayoría de personas premiadas

quienes dan continuidad a estos proyectos hoy en día

por lo tanto de que el número de mujeres empresarias nominadas y premiadas será creciente en todo caso reitero que comparto su preocupación señora arana

también las asociaciones que toman parte y el conjunto de las empresas vascas

asociaciones patronales las organizaciones patronales como también la fundación fueran como son ellas las únicas que pueden presentar candidatos o candidatas

en todo caso el gobierno vasco está firmemente comprometido con la igualdad y es necesario reconocer el papel de las mujeres empresarias vascas y eso lo hacemos como gobierno en la medida en que nos corresponde con las propias asociaciones de mujeres empresarias es preciso incrementar sí su visibilidad y lo comparto

por su trayectoria profesional y por su trayectoria empresarial

y estoy convencido de que los recibirán el futuro eskerrik asko

reflejan el peso industrial reflejan también el peso de los sectores intensivos en conocimiento así como las capacidades de investigación

hablábamos hacíamos referencias al compromiso del tres por ciento global donde evidentemente el gobierno vasco por lo menos últimamente está aumentando

tenemos que alcanzar un tres por ciento para el dos mil veinte la pregunta es lo haremos porque también cuando comparamos valores o hasta cuando se comparan también con el resto del estado

también tenemos que comparar cuál es el peso específico de los datos

las del conjunto del estado español tiene un peso del quince coma cinco por ciento por eso las comparaciones se tienen que hacer entre iguales en europa tampoco tienen el peso

son del dos coma tres por ciento no se pone el mismo objetivo eslovaquia que tiene un objetivo de uno coma dos o alemania que tiene un objetivo de un tres por ciento en función precisamente

los datos de euskadi del uno coma ochenta y dos por ciento del producto interior bruto se van alejando no ya solo de la media europea porque también se alojan de los de la zona euro que son mayores del dos coma doce

y personal investigador y además tenemos que compararnos creemos nosotros siempre con los mejores alemania está muy cerca del objetivo del tres por ciento y sabe que lo hizo además fundamentalmente en dos etapas a finales de los noventa y la del dos mil los objetivos cómo se consiguen también con un gran esfuerzo en inversión público cierto y desde luego

creemos que tenemos una cierta comparación pero desde luego la cuestión es global

del veinticuatro coma cuatro qué vamos a hacer porque los datos también que tenemos los que tenemos en el informe de orkestra por ejemplo nos dice que más de la mitad de las empresas que realiza

ha disminuido el informe del eustat del panorama empresa vasca dos mil dieciséis también nos dijo

nivel tecnológico medio bajo y bajo o incluso que no tienen valor añadido llegan al setenta por ciento mientras que solo tenemos el veinticinco coma cinco por ciento en medio alto y únicamente el cuatro coma cuatro en actividades industriales de alto valor

les compete el planteamiento evidentemente lograrlo no está únicamente en sus manos

y además también preveo porque es habitual que me va a dar una panopla de nombres de programas

hasta el dos mil veinte pero la estrategia es básicamente la misma que desde los ochenta los nombres cambian pero las iniciativas poco

a realizar una política industrial que creemos que es fundamental replantearnos si queremos alcanzar

creemos que tenemos que diseñar una política industrial ahora acorde

por eso la pregunta es qué va a hacer este gobierno eskerrik asko eskerrik asko larrion andrea lehendakari jauna zurea da hitza

predecible o previsible la respuesta con la panopla de enumeración de planes pero no lo voy a hacer de la misma manera que digo que no es predecible ni previsible la pregunta cuando se formula de una manera y se sale luego al atril a decir otra cosa en todo caso creo que no hay discrepancia y mi opinión coincide con la suya

del presente y del futuro de euskadi y en los datos relativos a los que usted también ha hecho una mención de pasada pero relativos

tres componentes de inversión gobierno vasco cuando hablamos de nosotros da la impresión de que es al gobierno vasco a quien nos referimos y cuando hablamos de nosotros creo que en esta cuestión

y empresas el gobierno vasco sí ha incrementado la inversión cada año desde el primer presupuesto aprobado en el año

trescientos ochenta y seis cuatrocientos once y cuatrocientos treinta y tres millónes el año que viene y hemos comprometido incrementar esta cifra a un cinco por ciento cada año hasta al año dos mil veinte y el gobierno vasco va a cumplir

no olvidemos que los proyectos o parte de los proyectos de investigación vascos se financian a través de programas competitivos estatales

es la empresa la propia empresa y estos años las empresas han tenido que priorizar inversiones y gastos más a corto plazo en momentos en que afrontaban el riesgo de su propia supervivencia y esto hay que tenerlo en cuenta

y tampoco los niveles de inversión empresarial en investigación y desarrollo es necesario por lo tanto que la financiación privada empresarial que representa el sesenta por ciento del total

trabajamos juntos para lograrlo en el marco del plan vasco de ciencia tecnología e innovación hoy euskadi sigue siendo no obstante la comunidad del estado que más invierte en

guztioi como décimos en la justificación de la pregunta la semana pasada según se conoció la fecha del juicio contra los acusados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas por el simple hecho de serlo

el programa e te be uno egun on euskadi cedió casi media hora para dar voz a la abogada de varios de los agresores

y a varios contertulios todos ellos a favor de dichos agresores

etb dio un contenido a su programa de parte a favor de los responsables de una agresión que tiene unas connotaciones muy concretas una agresión

en primer lugar porque si le pregunto al consejero de cultura probablemente me diga que el gobierno vasco no tiene nada que decir y en segundo lugar porque usted se ha comprometido

con la deslegitimación de la violencia con la defensa de los valores democráticos de la convivencia y en esa defensa señor lehendakari consideramos que debiera utilizar usted y su gobierno todos los medios a su alcance y etb a través del contrato programa firmado con ello puede ser uno de esos medios y hay algo que nos preocupa

que etb en este momento es una correa de transmisión un portavoz del gobierno vasco por eso

que etb esté tomando este tipo de posiciones posiciones que además no son coyunturales que son estructurales y nos preocupa son estas las posiciones de su gobierno son estas sus posiciones señor lehendakari cómo valora que desde etb se haya fortalecido se haya reforzado
las posiciones de los agresores de alsasua cómo valora usted esas agresiones eskerrik asko llanos andrea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi lo siento señora llanos pero se va a tener que conformar conmigo creo señora llanos que no es al lehendakari

por decisión de este parlamento nuestro grupo público de radio y televisión tiene sus órganos de seguimiento y control y el gobierno no es uno de ellos

del que es usted miembro o en la comisión parlamentaria de e i te be

en primer lugar en el consejo de administración sus decisiones o sus deliberaciones se remarca mucho que sean discretas y que no se den a la opinión pública creo que esta cuestión es algo que debe de conocer la opinión pública pero además le diré

aporta el noventa por ciento del

de e i te be y lo aporta porque tiene un contrato programa con e i te be en el que se compromete entre otras cosas y cito literalmente a dar cobertura a los ejes informativos

otra forma de violencia parecida cree de verdad

del contenido del programa de que se haga un programa de parte a favor de los responsables de una agresión con unas connotaciones muy concretas cree de verdad que este programa se corresponde con los principios y valores que se deben defender en un medio público

que desde telemadrid se hubiera hecho por ejemplo un programa a favor de los responsables de la muerte de aitor

vergonzoso vergonzoso de la misma manera que nos da vergüenza algunos de los contenidos

que les da igual porque no estamos ante un hecho coyuntural estamos ante un hecho estructural hemos tenido que ver en etb como contertulios a etarras a etarras

de otros etarras etb en este momento ha abandonado los principios de la ley de creación del ente principios a favor de la convivencia principios a favor

y ante eso de verdad señor consejero no tiene nada que decir el gobierno vasco no tiene

yo creo en la autonomía de e i te be y voy a intentar ser respetuoso con ella no me identifico con quienes se pasan el día

para a continuación intentar interferir en ella todo el rato tampoco comparto la actitud de algún representante político de su partido

la televisión pública y hacer una tele nueva con gente normal eso es lo que ha dicho o sea que espero que no gane por el bien de todos y espero también que usted no considere anormales a todos los trabajadores de la televisión pública vasca

he pedido a la directora general que les pase la pregunta que usted no ha querido hacer en el consejo de administración por cierto

si quiere le paso la respuesta que me han remitido así tendrá usted información de primera mano para preparar

en cualquier caso hay tres puntos de esa pregunta de esa respuesta que quiero

en primer lugar dice la nota de e i te be el programa egun on euskadi no emitió ninguna opinión sobre lo sucedido entre un grupo de jóvenes de altsasu y la guardia civil

que el juez instructor ha formulado segundo el programa en ningún momento adoptó ninguna posición editorial sobre las funciones que a la guardia civil corresponde o no desempeñar y tercero en ningún momento se hizo referencia a la campaña alde hemendik que usted cita en su pregunta escrita que nos ha remitido hasta aquí la versión de la directora general de e i te be y de los profesionales que tienen la responsabilidad de hacer el programa egun on euskadi por si de verdad le interesa

el primero muestre un poco de respeto por la autonomía y la profesionalidad de los periodistas de e i te be y segundo no se apresure deje que los tiempos judiciales discurran y espere a que la justicia haga su labor antes de condenar a nadie

buenos días gracias señora presidenta señores consejeros señora consejera

de euskadi el proyecto de decreto por el que se establecen los valores estimados para los ejemplares de fauna silvestre

al tratarse de un proyecto de disposición reglamentaria que se dicta

el dictamen concluye que se dictamina desfavorablemente el proyecto de decreto dado que el gobierno vasco carece de competencia para llevar a cabo

proyectada señora consejera es criterio suyo aprobar disposiciones de carácter general aunque la comisión jurídica asesora dictamine que carece de competencia

decía usted que lo decía taxativamente además que el dictamen de la comisión jurídica asesora en este caso es preceptivo aun así

de una disposición de carácter general además del criterio de la comisión jurídica asesora se atiende el criterio de la oficina de control económico ambos criterios

que lleve como resultado un informe negativo no se tramita no prospera la tramitación de la que estemos comentando hasta en tanto no se haga la corrección

de la ley de caza del país vasco dice que

a las instituciones comunes de la comunidad autónoma del país vasco la disposición final segunda dice que el gobierno vasco en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley

en los que la propia ley le haya atribuido una habilitación específica para ello el gobierno vasco necesita habilitación legal específica para regular la materia de caza tales especificaciones las contempla la ley para regular los siguientes aspectos

cinegéticas la prohibición de cazar con determinados razas de perros la creación de una comisión de homologación de trofeos de caza y el censo de caza está demostrado que el gobierno vasco no está habilitado para regular los artículo sesenta y cinco y sesenta y seis esa hubiera sido la voluntad del legislador la ley contemplaría tal habilitación como lo ha hecho en los anteriores artículos y asuntos que le he dicho por lo tanto señora consejera me da la impresión que usted hace oídos sordos al dictamen desfavorable de la comisión jurídica asesora le da igual

y además me ha dicho usted y me ha remitido a lo que dice la oficina de control económico la oficina de control económico en la ley de desarrollo de sostenibilidad energética o de sostenibilidad le ha dicho

a lo que decía la oficina no ha hecho caso y no ha remitido un informe económico en las condiciones que le pide la oficina de control económico no tiene límites su

a diestro y siniestro para luego desatender sus responsabilidades como veíamos en el anterior pleno de control no ofertando los cursos que los certificados de especiales

competencia que reconoce en la memoria de los presupuestos año tras año que vino a decir que casi era yo la responsable de no ofertar aquello cursos verdad señora

impresión de que está perdiendo el oremus en algunos aspectos y como decía

de los otros órganos en este caso de los organismos forales de los territorios de las diputaciones y en otros casos del gobierno de españa que usted cuando puede

presidente andrea señora lópez de ocariz le viene a usted muy bien ponerse en esta tribuna y hablar de cualquier cosa que no era la pregunta que me estaba usted haciendo

fueron las propias diputaciones forales las que solicitaron al gobierno vasco la tramitación de esta disposición fueron las propias diputaciones forales señora lópez de ocariz no estaba usted en la reunión verdad sabiendo que la competencia además de las diputaciones

de las mismas sin embargo durante la tramitación sí es cierto que la comisión la cojua ha dicho

dado que no es una competencia del gobierno vasco como bien sabíamos y en ese caso había dos opciones uno paralizar la tramitación del proyecto y que cada diputación en base

o como segunda opción continuar adelante con el proyecto en el caso de que cada una de las diputaciones delegara esa competencia de forma taxativa en el gobierno llegado este momento había que tomar una decisión y se ha tomado la decisión de que cada diputación tramite su propio decreto que sea de forma conjunta que sea una triple tramitación respetando el espíritu de lo que se había previsto

tengo que decir que el gobierno ha cumplido con su obligación de coordinación atendió a la voluntad de las diputaciones forales y en ningún caso por favor el tema de la usurpación puede quedar un poco ridículo en este caso no ha habido

van a ser ellas las que van a tramitarlo no hablamos de usurpación pero sí de exigencia de que las correspondientes atribuciones y competencias sean

sean transferidas a la mayor brevedad ya que estamos hablando de transferencias no pretendo usurpar nada simplemente que se cumpla el estatuto de gernika eskerrik asko

de competencias pero sí me gustaría nos gustaría a nuestro grupo preguntarle por un acuerdo de esta cámara que usted conoce bien en relación a la empresa euskotren y a la cuestión del mantenimiento de las unidades móviles y del material móvil de la empresa euskotren

se aprobó por este parlamento venía motivado por la preocupación y por la movilización de los propios trabajadores de la empresa pública que ven en riesgo su futuro ven en riesgo el futuro del mantenimiento de su carga de trabajo con el personal propio de la empresa

que dos años después de aquel acuerdo de este parlamento aquellos acuerdos no se han cumplido en la mayoría de la parte de aquel acuerdo y por lo tanto mi pregunta es por qué razón no se cumplen aquellos acuerdos

errepikatzen como usted decía en sesión celebrada el dieciocho de febrero de dos mil quince se aprobó la proposición no de ley a la que usted hacía referencia pero no solo ha ocurrido eso a partir de ahí el ocho de junio de dos mil quince como estoy segura de que usted también conoce

alcanzó un acuerdo con el comité permanente que actualizaba el acuerdo de dos mil diez

y garantizaba por una parte la plantilla existente en aquella fecha además de un compromiso para el dos mil dieciocho y además hacía referencia al mantenimiento de unas determinadas unidades la serie novecientos

aquello hizo además que la parte social dejara a un lado el problema de conflictividad laboral que existía y por tanto la pnl está perfectamente cumplida eskerrik asko

bien yo he hecho la pregunta oral porque la respuesta por escrito pues no nos

saber no es cierto que aquellos acuerdos se cumplieran además de que no hablaban solo de eso y el hecho de que nosotros estemos hoy aquí preguntando por esto que viene motivado lógicamente por la preocupación de los trabajadores que sigue vigente hoy en día es la prueba de que aquellos acuerdos no se cumplieron es cierto que hubo un nuevo acuerdo con los sindicatos

y por el cual ya no se podían cumplir los acuerdos también firmados por el gobierno vasco en dos mil diez que nunca se cumplieron pero es que estos acuerdos firmados nuevos acuerdos con los sindicatos donde ya se dejaban pelos en la gatera

y los trabajadores están realmente preocupados porque están convencidos de que no se van a cumplir esos acuerdos establecen que para el año dos mil dieciocho es decir dentro de un mes habría una plantilla estructural de ochenta trabajadores o el noventa por ciento de ellos setenta y dos para el año dos mil dieciocho los plazos necesarios para cubrir esas plazas es ya prácticamente imposible que se puedan ejecutar por lo tanto los trabajadores temen que una vez más no se vaya a cumplir no solo el acuerdo de este parlamento

el acuerdo con los propios trabajadores y eso quita mucha legitimidad a la dirección de la empresa pública euskotren y en nuestra opinión también al departamento porque no cumplir los acuerdos a los que uno es capaz de llegar pues quita legitimidad

que ustedes aseguran que se ha dado la formación necesaria a los trabajadores para situarse en el futuro dos mil diecinueve en cualquiera de los escenarios posibles y que en la empresa tome una decisión en cualquiera de los escenarios posibles uno de esos posibles escenarios

de los trabajadores que se encargan del mantenimiento de material móvil de la empresa pública euskotren porque es algo que no nos inventamos sino que ya está pasando a día de hoy

están trabajadores de subcontrata de la empresa suministradora

pero son los trabajadores que están haciendo y están sustituyendo progresivamente la carga de trabajo de los trabajadores propios por lo tanto estos trabajadores están muy preocupados y en nuestra opinión

pudiera realmente decir que no es así pero a día de hoy trabajadores de una subcontrata de una empresa privada están haciendo el trabajo de los trabajadores públicos además en las infraestructuras públicas pagadas por todas y por todos y el conflicto con los trabajadores no se ha acabado

pero ese acuerdo no se ha cumplido y parece que no se va a cumplir los trabajadores están muy preocupados y seguramente la conflictividad va a volver dentro de poco eskerrik asko eskerrik asko

señor hernández me decía que los trabajadores han dejado pelos en la gatera

ambas partes para conseguir llegar a un acuerdo como usted sin duda sabe en cuanto al compromiso firmado en dos mil dieciocho ha hablado usted de la plantilla mínima estructural de ochenta personas así es para el trabajo en el área de mantenimiento y material ferroviario todos en niveles de convenio colectivo

de tener cubierto el noventa por ciento de dichas vacantes estructurales es decir al menos setenta y dos que estarán cubiertas con personal fijo eso es lo que se acordó

que una vez finalice el actual contrato de mantenimiento que también se sabía que existía de la serie novecientos los trenes alcancen el plazo

no el de ciclo corto que es el que tenemos ahora esta sea realizada por su personal propio

por una parte si usted analiza bien los presupuestos de euskotren en los presupuestos de dos mil dieciocho que han sido aprobados por el consejo de gobierno y remitidos

de ese proyecto de presupuestos figura el incremento de la plantilla de mantenimiento móvil ferroviario hasta los ochenta puestos que estaban fijados está ahí

con todo ello queda en evidencia que la voluntad en la firma del contrato en la firma del convenio colectivo se está cumpliendo y se va a continuar cumpliendo y en estos momentos en la apertura de la nueva gestión del nuevo convenio colectivo también se cumplirán todos y cada uno de los acuerdos que se alcancen esa es nuestra voluntad y en una empresa pública los puestos de trabajo deben estar asociados a una plantilla evidentemente pero también a un presupuesto

gracias presidenta señora otamendi estimamos

de convivencia podrían acceder al derecho subjetivo a la vivienda hasta dos mil veinticinco a día de hoy como usted sabe el gobierno gestiona

que está ocupado los medios que disponemos para atender al margen de la prestación económica de vivienda esta demanda son la rotación

la recuperación de ritmo de construcciones de viviendas sociales y alojamientos dotacionales estimada

al año y la captación de más viviendas desocupadas de propietarios particulares haga usted números y verá que parece difícil que salgan las cuentas

de la ciudadanía y la opción ideal sería el disponer de un parque público suficiente pero como no lo tenemos

y quienes tienen derecho a ellas eso sí siempre con unos criterios muy claros eskerrik asko

ni inventemos cuentos de miedo lo que buscamos son fórmulas para contar con viviendas suficientes

las necesidades de la demanda que tenemos en alokabide y el desarrollo

ofrecemos a los propietarios particulares una renta garantizada por su vivienda le parece mala a usted que lo hagamos si tuviéramos ofertas de los bancos para alquilar viviendas de su propiedad en las condiciones del programa bizigune le parecería mal a usted

por ejemplo elkarkidetza o itzarri o geroa o fondos de inversión que gestionan kutxabank o caja laboral pudieran invertir en promoción de vivienda social en alquiler a cambio de una rentabilidad garantizada moderada y prolongada en el tiempo le parecería mal

a las que nos referimos cuando estamos hablando de explorar nuevas vías para financiar viviendas sociales en alquiler y esto se les ha explicado a ustedes en las reuniones que ha tenido

con euskal herria bildu cuáles son los criterios a los que tendrían que ajustarse

uno hacer posible un incremento de la oferta de vivienda en alquiler sin disminución de patrimonio público dos que los costes sean razonables tres que la gestión del parque de vivienda siga siendo pública cuatro que la adjudicación de esos pisos las realice etxebide con los criterios establecidos para el conjunto en alquiler público cinco

de la renta a abonar por los inquilinos sea calculado y revisada como hasta ahora en función de los ingresos de la unidad familiar le parece mal les parece mal

unir alternativas y posibilidades el reto que tenemos es muy importante

todos los medios con los que podamos contar y disponer serán necesarios

ser razonables saber que los objetivos que nos marca la ley de vivienda son unos objetivos muy ambiciosos

tanto del presupuesto por supuesto sí también contando con las posibilidades que nos puede

en alcanzar esos objetivos porque en definitiva lo importante es atender a las necesidades de la gente y poder poner en el mercado

azpiazu jauna egun on bueno hoy intentaré ser breve y ceñirme al impuesto de sociedades ya que

el portavoz de nuestro grupo parlamentario lander martínez pues solicitaremos

un pleno monográfico de fiscalidad en el que podamos abordar más asuntos

a nadie en este parlamento se nos escapa la importancia que tiene en una democracia una fiscalidad justa y una fiscalidad progresiva tampoco creo que les descubra nada nuevo ya lo decía

a principios del siglo pasado podemos tener democracia o riqueza concentrada pero nunca podremos tener ambas todo tipo de informes

señalan algo incuestionable que en euskadi al igual que en el resto de países de la ocde con la injusta que se ha hecho hoy de la crisis hoy en día las grandes fortunas

y están concentradas en menos manos uno de los principales instrumentos que tienen los gobiernos democráticos para hacer frente a esta injusta realidad

la política fiscal es decir los impuestos que paga la ciudadanía y hay otra realidad también irrebatible en euskadi el gasto

lo soporta el capital lo soportan los y las trabajadoras en euskadi los presupuestos de nuestras instituciones los sostienen no los que más tienen sino una mayoría de vascos y vascas que cobran una modesta nómina a fin de mes este miércoles su gobierno llegó a un acuerdo con el partido popular para introducir unos cambios en la fiscalidad a cambio del apoyo

ayudan a revertir la situación anterior esos cambios en fiscalidad la respuesta es no e incluso los profundiza y no es la primera vez señor azpiazu que le preguntamos por esta cuestión de hecho

estábamos de acuerdo en que era necesaria una reforma fiscal en profundidad pequeños cambios que era necesario subir la presión fiscal en el impuesto de sociedades ya de por sí según usted mismo más bajo que en el resto del estado o que en europa sin embargo señor azpiazu usted

han hecho justo lo contrario no solo de lo que decían sino de lo que necesita euskadi y su economía ustedes han preferido claudicar

y han dejado que impongan sus reglas de juego por eso han aceptado bajar el impuesto de sociedades a las empresas tal y como decía

pero es que ha sido usted quien desde hace más de seis meses lleva diciendo una y otra vez tanto a confebask como a cebek que era necesario incrementar la presión fiscal en el impuesto de sociedades usted

intuyo que a usted tampoco le gusta pero hoy tiene que defenderla aquí

la presión fiscal del impuesto de sociedades en euskadi es escandalosamente baja representa un uno coma siete por ciento del producto interior bruto mientras que en el estado representa un dos coma cuatro por ciento y en europa un dos coma seis por ciento y este problema viene de lejos

en ese momento el impuesto de sociedades aportaba un catorce coma siete por ciento de lo recaudado por las haciendas vascas y en el dos mil dieciséis fue solo

y encima ustedes van a bajarlo más señor azpiazu los datos son verdaderamente perturbadores el tipo efectivo del impuesto de sociedades en euskadi es del diecinueve coma seis por ciento un tipo efectivo lejos del nominal

con el que contamos en la actualidad pero ustedes encima van a bajar el tipo nominal sé señor azpiazu que usted está de acuerdo conmigo

como decía incluso como respuesta a la patronal vasca o a la patronal vizcaína y tenían ustedes la oportunidad de cambiar todo esto

y usted señor azpiazu tenía la voluntad de hacerlo pero le han torcido el brazo y se lo han torcido el partido popular la patronal y su enemigo intimo el señor rementeria tenían la oportunidad y han preferido optar por el camino

señor azpiazu así como le aplaudí cuando fue usted una de las primeras personas que abrió el melón de la reforma fiscal en euskadi

reforma fiscal justa redistributiva y progresiva contasen con nuestro grupo parlamentario tengo que decirle

con el partido popular el objetivo del partido popular siempre ha sido muy claro

en esta materia nunca se han escondido ni han intentado confundir

su intención siempre será que se bajen los impuestos a los que más tienen y que las grandes empresas cada vez paguen menos es decir menos presión fiscal para aquellos que puede pagar más y entonces

porque el mismo consejero que cree que se debe incrementar la presión fiscal en el impuesto de sociedades firma un acuerdo con el portavoz económico del partido popular que quiere reducir la presión fiscal y así lo ha manifestado por activa y por pasiva el señor damborenea le diría algo

así que no perdamos el tiempo con ellos señor azpiazu

sobre los efectos que el acuerdo alcanzado tendrá en la política fiscal de este país porque

cuando dos personas que hace tres meses pedían exactamente lo contrario ahora se sientan en una mesa junto a la señora berriozabal del partido nacionalista vasco y firman no se termina

y también está ahí la señora castelo que por casualidad también pasaba

pero no deja de tener retranca que hace solo un mes

dijeran que nunca aceptarían la rebaja del tipo del impuesto de sociedades que era una línea roja y mira tú por dónde mira tú por dónde señor azpiazu termino

con esta rebaja fiscal que han acordado ustedes con el partido popular la presión fiscal del impuesto de sociedades va a ser mayor o menor que hasta ahora es decir las empresas van a pagar más o menos por sus beneficios

legebiltzarkideok señor bollain dos previas

no enemigos además hay solo en guerras el señor rementeria es el diputado general de bizkaia y además da la casualidad de que es amigo mío otra previa dice han firmado ustedes el presupuesto o

con el partido popular sí lo hemos firmado pero porque ustedes no han querido firmar ningún acuerdo con el partido nacionalista vasco ni con este gobierno para apoyar el presupuesto

son cuestiones previas desde luego si la cámara tiene a bien

de que con ustedes es muy complicado hablar o al menos es difícil entenderse

y no nos hemos entendido vamos a ver si esta interpelación nos sirve para ello

de que este pasado martes se ha llegado a un acuerdo en materia fiscal entre el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular

a las juntas generales de los tres territorios históricos a los efectos de aprobar las correspondientes normas forales bollain jauna

lurralde historiko batzar nagusietan porque es ahí donde se deben tomar las decisiones relativas a la fiscalidad y sería ahí donde usted o mejor

a las cuestiones por la que usted me interpela hoy aquí el pacto fiscal alcanzado

de la sociedad vasca y garantiza que podamos seguir prestando los servicios públicos y promoviendo la reactivación económica de euskadi voy a responder

y sobre esta misma cuestión los días seis de octubre y tres de noviembre

que aumente la recaudación y que explore posibilidades de incrementar la presión fiscal en el impuesto de sociedades es un hecho como ya se lo he recordado al inicio de mi intervención

de nuestra normativa fiscal que tomará cuerpo en breve y le puedo asegurar que las instituciones que conforman el órgano de coordinación tributaria y sus representantes

que reportará no solo certidumbre fiscal que también sino recursos que tanto a usted le preocupan y a mí también señor bollain

juntas generales la evaluación de la reforma tributaria aprobada a finales del año dos mil trece

entre los mismos partidos políticos que ahora acaban de acordar esta actuación tributaria

y el partido popular también anunciaron que las tres diputaciones forales estaban trabajando conjuntamente en el diseño del proyecto de norma foral de medidas tributarias que ajustaría y mejoraría la normativa foral actual

todo este trabajo ha dado sus frutos la reforma incorpora medidas de diferentes impuestos

lo que se pretende es garantizar el equilibrio entre un impuesto que debe tratar de incentivar la actividad económica y generar el empleo de calidad por un lado y garantizar la principal función que corresponde al impuesto que es

la de recaudar por otro esto ya lo he explicado en anteriores ocasiones

creo que es importante aclarar que este impuesto se compone de diferentes elementos siendo efectivamente el tipo nominal lo ha dicho el lehendakari esta mañana a su portavoz

no es el único elemento ni el que decide la recaudación de las haciendas flaco favor hacemos a la sociedad si como representantes públicos no hablamos claro

es cierto en el que existe una tendencia de quedarse con las cifras redondas

el veinticuatro pero también cierto es que el tipo nominal del impuesto

es decir con lo que realmente pagan las empresas por sus beneficios

que son las que permiten incrementar o disminuir la recaudación final

históricos gracias al acuerdo adoptado esta semana siguen las tendencias europeas actuales sobre la fiscalidad más justa y eficiente

berdintsuago eta zuzenago bat lortzeko todavía pueden ustedes sumarse al acuerdo

que lo hagan es bueno para euskadi de verdad creen ustedes que nosotros la apoyaríamos si no fuera bueno para euskadi

fiscalidad justa y eficiente vienen repitiéndose una y otra vez desde las instancias europeas

además de cambiar el tipo nominal mediante el acuerdo se introduce una serie de medidas con el objetivo de incorporar al ordenamiento tributario foral la regulación acordada de la unión europea entre ellas la más importante la incorporación del modelo al ordenamiento tributario de la regulación contenida en la directiva

de doce de julio de dos mil dieciséis por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior

siempre con el objetivo de cumplir con las obligaciones derivadas

la erosión de las bases imponibles y el traslado artificioso de los beneficios empresariales nos preocupan esas cuestiones y espero que a usted también

también en el ámbito europeo así se limita la compensación de bases imponibles negativas se limita la aplicación de deducciones

se adecua la reducción por creación de empleo vinculando a la calidad del empleo y a su salario son tan solo algunos ejemplos

que pudiera suponer la bajada del tipo nominal se ha focalizado el debate tanto político como mediático en el tipo nominal del impuesto para bien

pero valoremos como lo valoremos hemos de ser conscientes de que la reducción del tipo nominal puede generar unas expectativas positivas en las empresas que permitan afincarlas en el territorio por una parte e impulsar

por otro creo que también eso le interesa a usted el afincamiento de las empresas y la creación de actividad

son de enorme importancia para euskadi no podemos señor bollain ni debemos caer en planteamientos fiscales simplistas

de la importancia de que nuestras empresas inviertan y contribuyan al conjunto

en euskadi el acuerdo es bueno para la patronal

el acuerdo es bueno para una minoría de personas en euskadi que son los que más tienen

no es bueno para la redistribución de la riqueza este acuerdo no es bueno para una gran mayoría social que vive cada vez en peores condiciones aquí en euskadi mire señor azpiazu cuando nuestro grupo parlamentario planteó el año pasado la necesidad de hablar sobre la reforma fiscal sobre fiscalidad

tanto usted como el lehendakari nos dieron un no rotundo un no rotundo que una cosa eran los presupuestos y otra cosa era la fiscalidad

qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión ahora qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión podrían haber pactado con las fuerzas progresistas de este parlamento

una reforma fiscal de verdad que incrementase la presión fiscal ya de por sí baja como hemos comentado antes que recae sobre los beneficios de las empresas sin embargo han decidido seis meses después con el partido popular y con su ansia

a aquellas personas que más tienen y señor azpiazu sinceramente le digo hay algo en este acuerdo que no entiendo y de verdad se lo digo no lo entiendo y no lo entiendo y que usted no conteste a lo que le pregunto

y acertarás y no lo entiendo señor azpiazu porque insistía usted justo antes de verano y citó literalmente en la necesidad de aumentar la presión fiscal en el impuesto de sociedades para mantener los servicios públicos y sin embargo sus socios en este acuerdo el partido popular

en la necesidad de realizar justo lo contrario bajar los impuestos a las empresas con beneficios y ahora usted no me contesta si sube la presión fiscal o si la bajan y no lo hace porque usted no quiere admitir en esta cámara ante este parlamento que la presión fiscal

va a verse mermada señor azpiazu decía el señor oyarzabal el mismo miércoles que han logrado convencer decía convencer al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi de la necesidad de bajar la presión fiscal en el impuesto de sociedades

podría contestarme usted es verdad lo que dice el señor oyarzabal y han claudicado ante el partido popular

pactando una rebaja en la presión fiscal señor azpiazu porque si no

y sin que sirva de precedente no creo que sea el partido popular porque

tampoco ha mencionado la presión fiscal de verdad señor azpiazu es incomprensible y no lo entiendo por qué usted no me ha contestado

en la presión fiscal del impuesto de sociedades señor azpiazu es absurda la firma de un acuerdo fiscal con el partido popular sin que usted sea capaz de contestar en esta cámara qué efectos tendrá el mismo es absurda

de un acuerdo fiscal con el partido popular sin que exista un informe del órgano de coordinación tributaria al respecto tributario perdón

usted no me ha contestado porque no quiere admitir ante esta cámara que esta vez han pactado sacar los presupuestos adelante con el partido popular a cambio de una rebaja fiscal señor azpiazu usted sabe tan bien como yo que el partido popular se ha congratulado por este acuerdo fiscal y usted no me contesta

han pactado los presupuestos con el partido popular de una rebaja fiscal sí es una rebaja fiscal a las personas que más dinero tienen y usted sigue sin contestar porque no quiere admitir ante esta cámara que es precisamente eso lo que han pactado con el partido popular

señor bollain usted dice lo mismo independientemente de cuales sean las medidas o cual sea el contenido del acuerdo

la conversación y el debate para tratar de llegar a un consenso yo me congratulo del acuerdo

en el órgano que se debe alcanzar y ahora se debe tramitar a través de las cuentas generales

más recursos públicos con lo cual si da más recursos públicos se entiende que la presión fiscal va a ser superior

en inversión y va a dar más empleo yo creo que eso es bueno se lo he intentado explicar antes y no sé si lo ha entendido porque usted tenía el discurso preparado para decirme que este es un mal acuerdo con el partido popular

entre los partidos que pueden alcanzar acuerdos y le vuelvo a repetir

es muy importante tras el acuerdo de este martes se acuerda proponer a las juntas generales para su aprobación la reducción de los tipos nominales del veintiocho al veinticuatro para el tipo general del veinticuatro al veinte para pymes esta reducción además

y en aras a continuar garantizando la estabilidad en la recaudación del impuesto de sociedades

incrementarla se ha acordado intensificar las limitaciones que ya estaban presentadas en la exposición pública e incluso adoptar

nuevas medidas es decir las medidas que se han acordado los partidos políticos y que deberán aprobarse en juntas generales permitirán en euskadi tener un tipo nominal del impuesto de sociedades atractivo

superior y en consecuencia incrementar la recaudación del impuesto es claro incrementar del impuesto un tiempo efectivo superior en cualquier caso la evolución de la recaudación del impuesto sobre sociedades

es precisamente que esas empresas tengan beneficios por lo tanto se ha pretendido equilibrar la balanza del impuesto de sociedades hacia una fiscalidad más justa moderna

y acorde con los estándares antielusión europeos pero sin que por ello perdamos atractivo

reitero el siguiente mensaje el pacto fiscal alcanzado es sólido realista y positivo ya que nos da estabilidad que es un bien común de la sociedad vasca y garantiza poder seguir

y también es muy importante para todos contar con unos recursos adicionales

unas políticas públicas que son demandadas por la ciudadanía y que han de ser provistas por las instituciones públicas satisfacer ambas cuestiones es decir generar expectativas justas para las empresas sin que ello suponga una merma de recursos tributarios son nuestros objetivos muy al contrario que supongan unos recursos públicos adecuados para afrontar las políticas sociales

y es el objetivo y es el objetivo de los cambios pactados en el impuesto de sociedades por lo tanto yo considero sinceramente que es un buen acuerdo y es una buena reforma fiscal

imprescindible señor bollain ahora voy a seguir con la siguiente interpelación quizá algunas de las cuestiones que le pueda

el pib de la comunidad autónoma estimado para el dos mil diecisiete

un diez por ciento más que en el dos mil siete pero ese aumento de la riqueza no se ha traducido en una mayor recaudación

restando esos ingresos excepcionales que ya hemos hablado de ellos es igual a la del dos mil siete y si nos fijamos de la recaudación del impuesto de sociedades tan manido impuesto de sociedades en el dos mil siete era de

y diez años después con una economía en crecimiento según los datos del gobierno vasco

más de ochocientos noventa millónes menos de recaudación mientras la recaudación en el irpf o el iva sube como no podía ser de otra manera

lo que usted mismo ha venido diciendo aquí en el parlamento y en múltiples intervenciones públicas intervenciones en las que no ha dudado en reclamar mayores ingresos fiscales

datos que un año más quedaban muy lejos de las previsiones iniciales usted mismo indicó que existía margen de maniobra para subir algunos impuestos decía usted que la presión tributaria no es mayor que en el resto de españa y es menor que en europa por lo que se podría pensar que hay una vía para hace algo palabras textuales

de aumentar la presión fiscal para sostener los servicios públicos que usted mismo calificaba como una reclamación de las y los ciudadanos que la administración vasca encuentra dificultades para entender la demanda que existe de atender gasto social educación sanidad como consecuencia de los años de la crisis

públicos y usted decía no somos ogros sino que cuando te encuentras con este problema lo lógico es pasar la boina egia da zuk esandakoak

azalduz sozietate zergaren tasa nominalean jaitsiera funtsezkoa ikusten zuen bere ustez con la situación actual las empresas que estudian ubicaciones para implantarse

oinaztura handi eta euri gutxi sailburu pero poco duró ese

para contentar al pp a confebask y a un grupo de prensa que ha estado meses haciendo campaña a favor de la rebaja del impuesto de sociedades y en esas estamos cuando en una vuelta de tuerca más donde dije digo digo diego

del impuesto de sociedades eso que había sido durante meses línea roja para el partido socialista incluso un error

algo totalmente contrario a lo reclamado por usted mismo al inicio del año para garantizar servicios públicos se convertía en la buena nueva de la fiscalidad

con eso pactan también modificar el impuesto de patrimonio bajándolo por supuesto ya que acuerdan aplicar la escala de bizkaia en los tres territorios la escala más favorable

envuelto en un colorido y bonito papel de regalo de deducciones más estrictas para las empresas y evidentemente con un gran lazo de garantía de recaudación pero eso

porque no es creíble no es creíble que la patronal se felicite por la reducción de la tasa del impuesto de sociedades o que el pp firme lo que siempre ha reclamado

que las empresas no van a pagar menos impuestos ante estos apaños fiscales que han pactado ustedes

algún grupo de comunicación que llevaba meses haciendo campaña como antes he dicho porque está fuera de la realidad incluso ugt y comisiones obreras nada sospechosos de ser de euskal herria bildu

en contra de esta propuesta de apaño fiscal y esta es la situación en la que estamos señor consejero según leímos en prensa estos días usted dijo que le parecía perfecto que pnv y que pse hayan acordado rebajar el impuesto de sociedades y ha incidido

para las empresas para la recaudación y la financiación de las políticas públicas

baina ez da posible izango las reformas acordadas se han consensuado primero como decía entre las instituciones

dos que formamos parte del gobierno y un tercero que está en la oposición y es lo primero que quiero destacar y darle el valor que merece

el grado de acuerdo que hemos logrado entre instituciones primero y entre partidos políticos muy distintos después ni es una cuestión menor ni estamos ante un nivel de consenso fácil de conseguir

en el contexto debo manifestar que se trata de una reforma

el gobierno ha incorporado sus aportaciones en orden por ejemplo a la adopción de nuevas medidas para evitar la evasión de elusión fiscal

o de la unión europea como acabo de apuntar y es sabido por todos

no podía ser de otra forma a la vista de la aritmética de las mayorías y minorías que operan en nuestras instituciones y si no queríamos que las reformas se quedaran en papel mojado así lo teníamos que hacer por tanto desde la perspectiva institucional

ante unos acuerdos cuya importancia estriba en el hecho de que van a dotar de estabilidad al país ya lo he dicho

que a nadie se nos escapa constituyen factores básicos para el positivo desenvolvimiento de la economía

de una propuesta que cuente con más apoyos de la que tenemos encima de la mesa qué se puede hacer entonces

las reformas acordadas como acabo de explicar nos van a permitir cumplir con los dos objetivos primordiales que en este ámbito nos hemos fijado en el programa de gobierno por un lado van a propiciar la suficiencia financiera del gobierno y del conjunto de las instituciones de euskadi

y mejorar las políticas públicas y los servicios públicos esenciales

de nuestro tejido productivo lo he reiterado muchas veces pero es que es así en este sentido permítame que les diga

haciendo abstracción de que el tipo nominal puede estar y de hecho está afectado por otras variables que operan sobre la liquidación del impuesto y de que todo ello en conjunto es a la postre lo que resulta el tipo de

también sobre esto acabo de hablar pero por decirlo lisa y llanamente se baja el tipo nominal sí

determinadas exenciones deducciones y bonificaciones

con finalidad vinculada a la actividad económica de la empresa se adecua la deducción por creación de empleo vinculándola al empleo de calidad

son solo algunos de los ejemplos de esta reforma

no se cuenta porque entonces algunas tesis se quedaría sin argumento y hay quienes se tendrían que enfrentar a otro problema cómo explicar a la gente su oposición a estas reformas

ambos señor bollain y señora pinedo en la vertiente de la recaudación tributaria aumentar la recaudación mediante el incremento

mi intención respecto a la recaudación existen ambos y ambos dan por hecho que la reforma acordada va a suponer una merma

hay que decir con claridad que esto no tiene que ser así no tiene por qué ser así y no va a ser así si las reformas coadyuvan a un incremento de la actividad económica también además de las propias medidas y estas a su vez a un crecimiento del empleo y de la calidad del empleo la recaudación fiscal no se va a ver afectada negativamente

en concreto en la combinación de la positiva evolución prevista a la economía con las modificaciones tributarias pactadas

emprender procesos de reversión o acometer dinámicas de adecuación salarial por ejemplo que redundarán también positivamente tanto en la ciudadanía

como un círculo virtuoso por todo ello reitero aquí que la reforma fiscal o las modificaciones fiscales

la recaudación y así consolidar y optimizar en su caso las políticas y los servicios públicos esenciales que este gobierno está firmemente

en especial los ámbitos de la salud de la educación y de las políticas de cohesión social desde este punto de vista resulta insostenible afirmar que una reforma que para las instituciones vascas supondrá una mayor disponibilidad de recursos vaya a implicar la realización de recortes presupuestarios

es cierto sin ir más lejos si se analiza el proyecto de presupuestos para el año

ejercicio el gobierno ha sometido a la consideración de esta cámara aún sin considerar las modificaciones fiscales se verá que los departamentos con mayores crecimientos presupuestarios en relación

y educación si se excluyen las dotaciones para hacer frente a la

relativo a la cuestión de la y ferroviaria entre ambos departamentos suman el sesenta y dos por ciento del incremento global

de la subida del gasto del gobierno este año y el que viene prácticamente dos

termino ya este apartado y lo quiero hacer resaltando un aspecto de la reforma fiscal que aunque esté pasando un tanto desapercibido en mi opinión tiene capital importancia

en los tres territorios históricos de euskadi en los elementos nucleares estructurales que regulan las figuras impositivas que se van a modificar como saben fuera

en más de una ocasión ha ocurrido que en nuestro sistema tributario no era el mismo en todos los territorios

igual traslación prácticamente igual traslación a todos los territorios históricos es la mejor forma que se me antoja para vertebrar el país con coherencia en este caso en el campo

gaur berriz ere mire señor consejero la realidad es que ante este apaño insisto no es una reforma es una apaño fiscal solo se alegra confebask

el partido popular y parte del pnv que a usted igual públicamente se lo dice pero en privado

no me extraña parte del pnv esta callado incluido usted o por lo menos dice lo que no decía hasta ahora

en contra esa es la realidad ustedes insisten en que esta reforma fiscal nos traerá más dinero etcétera etcétera mire

esta mal llamada reforma fiscal incluso por ejemplo una persona tan poco sospechosa de ser de eh bildu como el

son poco creíbles los argumentos para justificar la reducción del tipo impositivo que contempla la reforma

a quienes se le regala entre ciento cincuenta y doscientos millónes de euros y esto significa que a los ciudadanos vascos y vascas les va a costar entre setenta y cinco

eso lo decía un catedrático de hacienda pública y no lo digo yo y ustedes están en un papelón señor consejero usted el primero señor consejero

lo que usted venía defendiendo y lo que le han puesto encima de la mesa otros y ya

están satisfechos con la reforma fiscal pactada el anterior la buena la que

lleva el sello de los socialistas porque aporta una mirada progresista han firmado que han mantenido el tipo no sé si el tipo nominal o el tipo

y que no es momento de rebajar la presión a las empresas tres de noviembre hoy es uno de diciembre itxaso ha dicho que les hubiera alarmado en aquel momento les hubiera alarmado que la patronal hubiera aplaudido estas modificaciones cosa que ahora hace y ha lamentado que quizás alguien

les hubiera alarmado que la patronal hubiera aplaudido la modificación parece que

no solo alegra al partido socialista sino a gran parte del partido nacionalista vasco mire cuando hablan de que

este ahorro en la fiscalidad ergo van a pagar menos impuestos ahorro en la fiscalidad voy a pagar menos impuestos se queda dinero en el bolsillo de la empresa palabras del presidente de confebask y si el mercado lo pide quizás a lo mejor

pues evidentemente quizás ese dinero se empleará en inversión de creación de empleo

un hombre muy famoso en el estado no ya tal y es más

cinco euros de beneficio para que la recaudación quedara igual y el añadía ni las bodas de caná y yo digo ni en los mundos de yupi señor consejero ni en los mundos de yupi soy de otra época y la verdad es que

solo los impuestos y no porque el mercado vaya mejor que sí es cierto que va mejor pero no por sus actividades las empresas no van a invertir

maquinaria por el simple hecho de que por pagar menos impuestos tiene más dinero en el bolsillo

eso es otra cosa pero economía no señor consejero y usted lo sabe tan bien como yo usted lo sabe tan bien como yo y además bueno

insisto en que no es el momento de bajar impuestos a nadie a nadie impuesto de sociedades y el impuesto de patrimonio

lo que habían pactado ellos y lo que ellos buscaron y

aquellos eran otros tiempos y no había tantos puestos en el gobierno vasco que mantener

usted sabe que yo nunca he hecho tótem del tipo nominal y lo hemos hablado usted y yo nunca pero la realidad otros tótem del tipo nominal es que lo decían era una línea roja ustedes también y es más incluso algunos socialistas dijeron

lo conseguido en menos de quince días pues una semanita les ha bastado una semanita señor consejero

con una sociedad cohesionada con generar dinero para hacerlo porque usted sabe que

a los acuerdos que hemos cerrado entre los partidos que formamos el gobierno del partido popular y además no se confunda yo soy miembro del gobierno y miembro del partido nacionalista vasco a veces parece que quieren confundir las cuestiones me parece perfecto que no les guste es totalmente legítimo pero la cuestión es que tienen ustedes alguna alternativa tiene alguna alternativa que sea factible

y realista y muy importante tienen ustedes una alternativa que concite un grado de acuerdo mayor que el que representa la reforma pactada

sería extensible con visos de éxito en las juntas generales

baje de esa realidad virtual a pisar tierra los que gobernamos tenemos que pisar tierra

me temo que ni de una cosa ni otra me temo que ni tienen una propuesta alternativa

al conseguido por la reforma que ya se está planteando y refiriéndome a la fiscalidad y a la capacidad normativa que nos confiere el concierto económico no puedo concluir esta intervención sin aludir a las voces que desde comunidades autónomas limítrofes

de agravios comparativos de competencia desleal y es que en las últimas semanas estamos leyendo y oyendo cosas que nos tienen muy preocupados

ante tantas barbaridades y tantas medias verdades lo primero que resulta obligado hacer es denunciar

nos está tocando volver a asistir porque nadie

ha sido nominalmente superior al vigente en territorio común y sabe alguien en esta cámara de alguna empresa vasca que exclusivamente por este motivo se haya trasladado de euskadi a logroño o a burgos

habría de ocurrir lo que no ha pasado nunca podría seguir haciéndome preguntas acerca de cómo se invocan alegremente supuesto efecto frontera o del por qué este tipo de polémicas se suscitan

pero no es la cuestión la cuestión es que no volvamos a los tribunales en este caso al constitucional como consecuencia de las disposiciones de la ley orgánica uno barra dos mil diez

del tribunal constitucional y del poder judicial más conocida como la de blindaje del concierto económico o nos hemos olvidado ya de que

del impuesto sobre sociedades ya lo han perdido antes

les invito a que repasen la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de septiembre del año dos mil ocho a raíz de la cuestión prejudicial que le planteó el superior de justicia del país vaco porque el tipo nominal sobre el impuesto sobre sociedades era aquí del treinta y tres mientras que el vigente en territorio común era del treinta y cinco

fue totalmente totalmente favorable a nuestras tesis rebatió

por los recurrentes y se ratificó en su conocida doctrina azores en la que fijaron los criterios por los que la fiscalidad de una región diferente a la de su estado miembro puede hallar perfecto encaje en los tratados de la unión dando así carta de la naturaleza ante las instituciones europeas a la existencia de sistemas tributarios diferenciados

en función de una distribución asimétrica de competencias por todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor de las que ustedes señora pinedo son perfectamente conscientes y si no lo son

por todas estas cosas digo todavía se entienden menos determinados sentidos de voto en las cortes generales como lo que ocurrió hace

en euskadi hemos trabajado desde la aprobación del real decreto dieciséis barra dos mil doce

y así vamos a continuar trabajando la primera medida fue impugnarlo y adicionalmente hemos desarrollado diversas iniciativas legislativas para paliar sus efectos

a las personas en situación administrativa irregular y establecer compensaciones al incremento del copago farmacéutico como bien ha dicho fue recurrido por el gobierno de españa ante el tribunal constitucional que inicialmente declaró no ajustado a derecho lo relativo al incremento del copago farmacéutico

en cualquier caso como usted ha dicho hace escasos días hemos recibido la sentencia del tribunal constitucional concretamente el viernes de un primer análisis se desprende

se ven claramente mermadas cerrando la posibilidad de desarrollo normativo autonómico para configurar el sistema de acceso a las prestaciones sanitarias no obstante estamos realizando un análisis exhaustivo de la sentencia desde los servicios jurídicos del gobierno el objetivo claro de continuar garantizando las medidas para paliar el incremento del copago farmacéutico y el acceso universal a la sanidad pública en euskadi

por lo que han estado haciendo hasta ahora porque lo conocemos perfectamente le he preguntado

indarrean y qué es lo que van a hacer porque no lo que no podemos hacer desde luego es que cada vez que madrid nos dé un portazo la respuesta nuestra sea hacer un toc toc llamamos a la puerta venimos con este decreto o

porque esa es la relación que se está teniendo hasta ahora esa relación maravillosa de bilateralidad

es una unilateralidad real para recordarnos que cada vez que quiere y se nos ocurra sacar los pies del tiesto dejan de soltar cuerda para volver a tensarla

nos dirigen a su antojo por mucho que nos hagan pensar lo contrario

acaso no las invade el estado español día a día acaso no las invade

mire el gobierno vasco ha fracasado totalmente en la defensa del autogobierno desde que el tribunal constitucional haya suspendido el decreto sanitario no no se lo estoy diciendo a usted ni se lo estoy diciendo al señor urkullu no se equivoque estas son palabras literales que el señor urkullu cuando no era todavía lehendakari estaba diciendo le dijo al señor patxi lópez cuando él sí lehendakari supongo que hoy en día pensaran lo mismo que hace cinco años y tendrán las mismas preocupaciones que hace cinco años pero como yo no acuso yo pregunto
lo que le pregunto es qué van a hacer ustedes en defensa del autogobierno ante este nuevo ataque del estado español eskerrik asko blanco andrea darpón jauna zurea da hitza

pertsona guztien eskubidea bilakatzeko asmoz con este objetivo el gobierno vasco aprobó el decreto ciento catorce barra dos mil doce y aprobó también

con el objetivo de regular las ayudas destinadas a facilitar la adherencia de los colectivos más desfavorecidos a los tratamientos médicos

pero hoy sigue en vigor en enero señora blanco pagaremos

al segundo semestre del año dos mil diecisiete además como usted bien sabe no solo el decreto lo consideramos en vigor sino que recientemente

a las personas en situación legal de desempleo y a los perceptores de renta de garantía de ingresos en ambos casos con ingresos no superiores a dieciocho mil euros y los vamos a mantener señora blanco a ver si quitan ustedes la bandera española de los ayuntamientos

seguimos también defendiendo el carácter universal del sistema sanitario de euskadi y lo defendemos con acciones concretas laburbilduz

gracias de nuevo presidenta consejeros consejera señorías bien

hoy uno de diciembre hace seis meses que el parlamento aprobó una moción consecuencia de interpelación en la que se instaba al gobierno vasco a una serie de actuaciones en relación con las labores de expurgo de documentos judiciales

entre otras cosas la moción decía que se elaboren una serie de propuestas que remitan a la junta de expurgo para analizar los criterios los procedimientos de la eliminación de la documentación judicial

necesario que dichos criterios y procedimientos se basen en una valoración de los documentos que se materialicen para el esclarecimiento del calendario de conservación de las series documentales se hablaba de que el gobierno vasco en colaboración con la junta de expurgo estudiaría las medidas más oportunas para la adecuación y preservación en buen estado de los expedientes no expurgados y de los resúmenes de los expurgados a fin de garantizar la conservación de todos ellos de una manera adecuada se hablaba

de la valoración documental de la selección de documentos prioritaria seria los relacionados con los derechos humanos la memoria histórica y se hablaba finalmente de que había una recomendación

hasta que no se produzca dicha actualización de criterios y de procedimientos bien el presidente de la junta de expurgo que es a la vez el decano de los juzgados de bilbao mando la junta de expurgo mando al parlamento vasco una carta bueno respondiendo

esta moción y dijo que la suspensión se mantendría hasta el treinta de septiembre si mal no recuerdo ha pasado ya un tiempo

y habrán tomado algunas decisiones bien pues queremos saber todas estas cuestiones que tienen que ver cuál es el estado de la situación es decir se aprobó una moción se pidieron criterios una reflexión sobre la actuación de la junta de expurgo de

los expedientes judiciales porque había habido y se habían identificado importantes deficiencias en relación con la desaparición de algunas de esas cuestiones
y queremos saber cómo está a día de hoy la situación muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

presidente andrea legebiltzarkideok barrio jauna me pregunta por las actuaciones que estamos llevando a cabo en relación con el expurgo judicial

que este tema es importante para el gobierno y que estamos especialmente sensibilizados con el mismo como ya le indique desde la formación de este gobierno

y para el de justicia que también es competente en esta materia el parlamento vasco aprobó el pasado uno de junio una moción en la que se instaba a los departamentos de cultura y justicia del gobierno

y a elaborar una nueva propuesta de selección de los documentos para su presentación y en su caso aprobación en la junta de expurgo de expedientes judiciales de euskadi

se ha procedido a la suspensión del expurgo de los documentos judiciales hasta la aprobación de nuevos criterios y sistemas de selección

en dos mil cinco hasta la fecha sin que se haya constatado la destrucción de documentos de valor histórico destacado en la labor de expurgo realizada

se han analizado los sistemas con los que trabajan las juntas de expurgo de otras comunidades autónomas y del estado se ha elaborado un documento de diagnóstico y definición de criterios y que guían

caracterizados por su complejidad y por su carácter prioritario

se ha realizado también una valoración documental y se ha elaborado el calendario de conservación de once

en este trabajo están trabajando profesionales especializados en la materia y colabora con ellos el responsable del archivo del sistema judicial en el país vasco se está trabajando para terminar este mismo año la valoración documental y elaboración del calendario de conservación de las otras catorce series documentales

las propuestas de conversación de las veinticinco series documentales valoradas

del primer trimestre del dos mil dieciocho propuestas de calendario de conservación

series documentales identificadas y citadas para su aprobación y posterior publicación creo que estamos en condiciones de afirmar que no se ha destruido
ningún documento relevante eskerrik asko eskerrik asko

fundamental el documental el de las reflexiones el de los criterios que había que reelaborar o redefinirse se ha acabado usted ha hablado de un documento le solicitamos que

a la moción que realizó el parlamento vasco

también décimos que no sé si de la palabra será poner en duda

documentos pero entendemos que sí acuérdese usted que a la vez que la aprobación de la moción en el parlamento vasco donde se hablaba de esa suspensión temporal y de esa necesidad

veinticinco profesores de historia ponían el acento en un

que trasladaron a los medios de comunicación verdaderamente contundente la amenaza para la historia donde ponían también ellos de manifiesto ya lo hicimos en este parlamento en relación con la desaparición de algunos expedientes esa misma desaparición de expedientes y la ligaban a un grave problema

será una discusión pero si están hay que sacarlos porque ahí

con crímenes de eta que había desaparecido mucha de la carga documental de esos mismos y se ponía

para clarificar toda esa cuestión y desde luego si hay clarificación y si hay documentos
de nuevos criterios hay que enviarlos al parlamento vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

elaborado yo creo que bastante preciso que sin duda enviaremos al parlamento para su conocimiento la labor de análisis que se ha hecho es muy amplia mucho más amplia de las que existen en todos los ámbitos a nuestro alrededor por lo tanto creo que en cualquier caso ha sido buen ejercicio que traerá sus conclusiones

y aportaremos a los ámbitos correspondientes con respecto a la pérdida de documentos se había enfocado en uno

este asesinato se produjo el veintiocho de junio de mil novecientos setenta y ocho fue juzgado en la audiencia nacional que fue creada un año antes en fecha de cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete por lo tanto el expediente debería estar en la audiencia nacional

le hizo una demanda mayoritaria atendiendo

estas personas realizan su trabajo en unas condiciones laborales impropias por decirlo de una manera suave a las tareas que desempeñan y tenían una serie de peticiones laborales justas como incrementar la plantilla subrogar la plantilla actual

o un convenio adaptado al servicio que realizan hiru hilabete geroago apirilean legebiltzarrak berriz ere

lo único que ha hecho durante este tiempo ha sido mirar para otro lado e incumplir los mandatos que se le dieron por un lado no han incluido las peticiones que

tampoco han comprobado si la actual adjudicataria había cumplido o no las condiciones de adjudicación las trabajadoras del servicio han realizado múltiples denuncias diciendo que se han incumplido estas condiciones y ustedes

las trabajadoras han demostrado que lanalden la empresa adjudicataria no cubre todos los turnos al cien por ciento le han entregado un estadillo como este realizado por ellas mismas donde demuestran que no se cumple el número mínimo de personas estipuladas por turno ustedes no han querido hacer ningún informe al respecto les han demostrado que no existe

en técnicas de atención telefónica ni en lengua extranjera como se comprometió la empresa y que la empresa no ha destinado personal para atender en inglés o francés como en su momento estipuló cuando se le adjudicó el contrato ustedes no solamente no han hecho nada respecto a las peticiones

detectados por la plantilla en la nueva adjudicación para ello han contado con la complicidad del departamento de trabajo cuya representante no está aquí pero la interpelaré un día de estos para saber por qué fueron tan rápidos haciendo servicios mínimos del cien por ciento para la plantilla

la plantilla en marzo mayo y junio por incumplimiento de las condiciones laborales contratos mal hechos bajas no cubiertas en periodo de huelga

a día de hoy tenemos el concurso abierto para renovar el servicio y se han presentado tres empresas las trabajadoras en un alarde de buena fe y de implicación se reunieron con las tres empresas que optaban al concurso y les presentaron

para ver si estarían dispuestas a asumirlas dos de ellas dijeron que sí que no tendría ningún problema la tercera no respondió a quién se le ha adjudicado el servicio a la tercera a lanalden a la que ya estaba este martes pasado se le ha adjudicado a esa empresa

a la única empresa que no está dispuesta a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras quién está detrás de esta empresa lanalden para que esto sea así bueno

quién está detrás de lanalden es el gobierno vasco que es el accionista mayoritario de lanalden el departamento de desarrollo económico

es quién ahora mismo está explotando las condiciones laborales de las trabajadoras lanalden y el consulting bultz lan detrás del cual está cáritas y una familia muy cercana al pnv

esos son quienes están detrás de lanalden que es la empresa que se va a llevar la adjudicación del servicio

público privada que es poner el capital público al servicio del beneficio privado para que se lleve esta empresa contratos públicos con euskaltel con

esta es la empresa que se va a llevar el servicio esto además de ser una colaboración público privada mal entendida

y en peores condiciones y además no hace

a lo que las trabajadoras ahora mismo están dando a esta sociedad que es

a prueba de todas dudas una dedicación y un buen hacer a pesar de las condiciones laborales lamentables unos salarios indignos unos recortes hasta en las dietas de viajes

y atendiendo el servicio como si no pasara nada pero tengo que decir que la subcontratación

y que en este caso además quien está ejerciendo esa esclavitud es el gobierno vasco que luego habla de desarrollo humano sostenible o como le hemos oído hoy al lehendakari

a esas trabajadoras a ver cómo están cómo hablamos de cláusulas sociales y luego tenemos a cáritas detrás de esto

incomprensible lo que está pasando con estas trabajadoras incomprensible y lo que yo ahora le digo es

en el departamento para arreglar esta cuestión van a mediar para conseguir que la empresa adjudicataria establezca un convenio específico para esta actividad

en castilla y león tenía un convenio específico van a verificar con informes

van a tratar de que se imparta la formación específica que necesitan las trabajadoras de este servicio que antes era de un mes y ahora es de diez días cómo van a dar su servicio adecuadamente si cada vez tienen menos formación

como en su momento se estableció por parte de este parlamento que el incremento de la partida presupuestaria que va a este servicio vaya a incrementar los sueldos porque este concurso sale con casi seiscientos mil euros más que el de dos mil once

al bolsillo de las trabajadoras a mejorar sus condiciones o van a ir al bolsillo de lanalden

a quién se lo ha dado y en qué condiciones se va a desarrollar el servicio durante los tres años siguientes y de momento

eskerrik asko mahaiburu andrea señor becerra primer error que tengo que corregirle el servicio no está adjudicado ha referido usted que el martes pasado se adjudicó el servicio a una empresa primer error

señor becerra el pliego de condiciones para la contratación de los servicios de atención

incidencias al centro de coordinación de emergencias y al centro de gestión de tráfico de euskadi se publicó el pasado veintisiete de julio

de elaboración de informes de contrastes de información el anuncio de licitación se publicó en el diario oficial de la unión europea el veintinueve de julio y el treinta y uno de julio en el boletín oficial del estado tras superar todos los trámites exigidos en los procedimientos de contratación pública

señor becerra son muchos los informes los informes técnicos las cláusulas administrativas los procesos de tramitación que hay que ir cumplimentando paso a paso

de contratación y más en un proceso de contratación de estas características desde que el director de atención de emergencias y meteorología y la directora de

que se requieren para su correcta ejecución hasta la publicación de los pliegos nada ha estado al albur de la improvisación ni de la inconcreción

de redacción contraste y modificaciones de mejora hasta que el veinte de julio

cláusulas administrativas particulares del expediente emitido por funcionarios por funcionaria en este caso técnica de contratación cuatro días después el veinticuatro de julio se recibió el informe favorable de la oficina de control económico y el veintiséis de julio el consejo de gobierno acordó la autorización de la celebración de este contrato de servicios por un importe de cinco millónes doscientos veintidós mil euros ese mismo día el veintiséis de julio del dos mil diecisiete

orden esta consejera aprobó el expediente de contratación definitivo que tenía y tiene por objeto la contratación de servicio de atención de llamadas de emergencia y de tráfico de euskadi

de contar a la hora de su publicación con todos los informes preceptivos favorables tanto desde la oficina de control económico como desde la mesa y de la comisión central de contratación y de la propia dirección de gestión económica y de recursos generales además de los informes que acreditaban la idoneidad jurídica

las modificaciones vinieron motivadas por la publicación en el boletín oficial del estado en esas mismas fechas

retrotraía sus efectos económicos al uno de enero de dos mil quince y esto nos obligó a incorporar esas modificaciones en los pliegos de condiciones de la contratación se trataba de modificaciones que implicaban una variación en las condiciones laborales

y así con la incorporación de la nuevas clausulas salariales del convenio de referencia la orden

que yo misma firmé aprobó la modificación del expediente de contratación esas modificaciones se recogieron como del pliego de prescripciones técnicas de esta manera se garantizaba que las empresas licitadoras tuvieran conocimiento exacto de los costes salariales del personal acordados en el nuevo convenio de contact center

o puede deducir estamos ahora en pleno proceso de valoración de las ofertas en un proceso de

hemos realizado la adjudicación a ninguna empresa todavía yo creo que además en este sentido y en este momento no me corresponde pronunciarme ni emitir juicios ni valoraciones sobre las cuestiones relacionadas con el proceso de adjudicación tampoco me corresponde construir un relato

comentarle un relato con el que en primer lugar quiero recordarle que los procedimientos de contratación como el que nos ocupa participan diversos órganos del gobierno pertenecientes a otros departamentos

u órganos como digo de esos departamentos y su participación o aportación no es otra que la de velar por las garantías necesarias en la aplicación de los principios de transparencia libre concurrencia e igualdad de oportunidades

tiene el simple objetivo pero a veces parece que complejo objetivo de que comprenda usted y que comprenda su grupo

y que para eso hemos estado trabajando durante todos estos meses estamos empeñados en llevar a buen término esta contratación para que organizativa pública de atención a las llamadas de emergencia de tráfico y emergencias sean como son actualmente y así lo reconozco un servicio público útil un servicio de referencia indiscutible para la ciudadanía vasca

la contratación del servicio de atención de llamadas de emergencia y tráfico de euskadi que la dirección

tráfico del propio departamento gestionan y que lideran en el centro de txurdinaga y especialmente en días como

en el que las necesidades de atención a las llamadas de emergencia o a las llamadas de información sobre el estado de las carreteras pueden verse incrementadas

quiero decirle señor becerra que por muy loable que sea la voluntad política que por muy loable sea el acuerdo que se alcanzó aquí choca frontalmente con lo que es la legislación con lo que es la legislación básica que hay que a los contratos y por tanto creo que en un acto de responsabilidad por parte de su grupo lo que deberían es haber tenido en cuenta muy en cuenta si los
acuerdos que aquí adoptaron eran legales o no eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

créame señora consejera que muchas veces la legalidad en los acuerdos depende más de la voluntad de quien los tiene que aplicar que de otra cosa

y lo hacen por mil euros o menos con unas condiciones muchas veces que no el retén mínimo de servicios no hay el personal en sala que tiene que haber sin que se les paguen los desplazamientos a ellas mismas desde las otras capitales hasta bilbao etcétera etcétera eso lo pusimos de manifiesto ya en enero y no me voy a detener en ello lo que sí le puedo decir es que comprendemos perfectamente cuáles son los procesos de contratación

en lo que nos vamos a meter es en lo que ha habido antes del proceso de contratación y después

está todo perfectamente planificado ustedes han decidido no hacer informes para que no conste en ningún lado los incumplimientos que la propia plantilla les ha revelado pero es que tampoco están respondiendo a las denuncias que la propia plantilla les

de los incumplimientos flagrantes que ha tenido esta empresa en su desempeño durante los últimos años efectivamente no está completado el proceso de valoración pero en el proceso de valoración en los pliegos técnicos

tiene adjudicado el servicio tiene adjudicado el servicio prácticamente y yo lo que le digo es esta empresa lanalden entre dos mil doce y dos mil dieciséis es decir con

ha ganado tres millónes de euros tres millónes de euros de los cuales la práctica totalidad se han ido a dividendos a dividendos para el gobierno

para diferentes empresas privadas todo el mundo se ha beneficiado

concurso excepto las trabajadoras del anterior y yo lo que le estoy diciendo es en el próximo concurso en los próximos tres años

a qué bolsillo van a ir van a ir al bolsillo de las empresas

y esa es la parte siguiente cuando se haya adjudicado el concurso evidentemente la empresa tiene una relación con las trabajadoras pero sigue habiendo una tutela por parte del departamento

propio específico que ya existe en otros sitios que ya existe en otros servicios también de emergencias como por ejemplo el sector de ambulancias existe esa posibilidad y eso no tiene que ver con el pliego de condiciones técnicas señora consejera eso se puede hacer después y se pueden hacer muchas otras cosas como por ejemplo mejorar la formación certificar que eso lo pidió el parlamento también certificar de forma específica

verificar y eso va a estar durante los tres años entre manos de su departamento que se cumpla a rajatabla aquellas condiciones que lanalden se haya comprometido

todo eso no tiene nada que ver con el proceso de adjudicación no tiene nada que ver con los informes que tiene que haber con la contratación no tiene nada que ver señora consejera es una cuestión más de voluntad política que de otra cosa y no la han demostrado ustedes y todavía no acierto a saber

no fueran del departamento fueran algo ajeno porque las tratan de una forma tan extraordinariamente

no hubiera pasado nada porque usted se hubiera reunido máxime cuando el parlamento se lo pidió expresamente y eso

para que recondujeran la situación y no han sido capaces de llegar a eso entonces lo que sí le pediría es que reconduzcan la situación

a quién tienen que adjudicarle o a quién no tienen que adjudicarle el servicio pero se le adjudique a quien se le adjudique sobre todo a una empresa tan sospechosa a día de hoy como lanalden

lo que sí le pido es que en el próximo periodo de tres años no pueden ustedes hacer y tener la misma actitud que han tenido hasta ahora tienen que tener una actitud mucho más dialogante con las trabajadoras y desde luego una actitud mucho más fiscalizadora para con la empresa y el servicio que prestan gracias

explícita en mi primera intervención a la hora de dar cuenta de las garantías que debe cubrir y cumplir un proceso de contratación pública como

interpelación que me ha planteado usted ni el departamento ni la consejera ni la dirección de emergencias o la dirección de tráfico tienen en este proceso de contratación más papel que el que le corresponde por ley tratándose de un procedimiento de contratación pública ni con nuestra deliberación

actuación podemos contravenir la ley eso lo tenemos claro o interferir en los procedimientos que fijan las garantías de una contratación insisto una contratación transparente ajustada a los principios de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades

de condiciones que recogen bien las necesidades del servicio que garantizan los aspectos organizativos que aseguran el buen funcionamiento y que además

aplicar una política de personal justa y motivadora pero ajustándose siempre y ajustándonos siempre a la legalidad sin interferir en los acuerdos de convenio ni en otras cuestiones de política de personal o salarial

de negociación y ámbito de gestión o negociación sindical insisto ni el propio departamento ni siquiera este parlamento tenemos o tienen la potestad para imponer o tratar de imponer condiciones laborales salariales u organizativas que excedan nuestras funciones y menos

que no estén determinadas por la ley las normas de contratación usted sabe y lo ha dicho aquí son básicas usted ha dicho

la palabra no era la más correcta las he sufrido pero son básicas y por tanto de obligado cumplimiento

un brindis al sol unas propuestas que despertaron falsas expectativas en los trabajadores y en las trabajadoras y esa

de proteger ni defender los derechos de trabajadores y trabajadoras como le he dicho anteriormente estamos empeñados en llevar a buen término esta contratación y esta ha sido

a las cláusulas sociales adecuándolas siempre a las normas de contratación por eso hemos estado trabajando durante todos estos meses ha sido un trabajo arduo constante en estrecha relación con todos los departamentos organismos y direcciones afectadas somos

y al teléfono de tráfico garantice un servicio público útil un servicio que sea de referencia indiscutible para la ciudadanía vasca como lo viene siendo hasta ahora

esta es nuestra voluntad política que se ha visto reflejada en las bases también en relación con las clausulas sociales

bien definidos y así seguirán siendo disponemos de un servicio público que está atendido por un equipo de operadores y operadoras con responsabilidad con una experiencia profesional con un buen hacer también demostrado ahora se trata también de contratar

y de garantizar que este servicio siga siendo así se sigan haciendo las cosas bien y estoy convencida de que cuando finalice este proceso de adjudicación será así eskerrik asko

señora beltrán de heredia usted si yo le interpelo o le pregunto por el cuerpo de miñones usted juega con ventaja con mucha ventaja

pero usted en su caso concreto conoce el cuerpo de miñones muy bien porque es alavesa porque conoce muy bien el medio rural

creo que poco o nada o casi nada puedo contarle yo del cuerpo de miñones que usted no sepa pero quizás mis compañeros y por contextualizar la preocupación que nos ha traído hoy a la tribuna tenga que explicar que el cuerpo de miñones de la diputación foral de álava es la policía más antigua de españa

hay historiadores que dicen que sí y otros dicen que no pero bueno para nosotros desde luego es la más antigua de toda europa es una policía que aunque tiene su origen en la baja edad media fue creada a finales

del siglo dieciocho y tiene una estructura que se mantiene prácticamente sin cambiarse desde mil novecientos treinta es una policía singular que aguantó el tirón de la guerra civil de la terrible guerra civil que se vivió entre mil novecientos treinta y seis y mil novecientos treinta y nueve y más aún

que trataba de borrar todas las singularidades de todas las peculiaridades de los territorios forales y aguantó toda la dictadura incluso aguantó el embate del terrorismo cuando en mil novecientos ochenta el bastardo terrorismo de eta asesinó a jesús

el que era jefe de miñones en enero de mil novecientos ochenta matándolo aquí en vitoria muy cerquita de este parlamento al otro lado de la catedral ese cuerpo de miñones creado esa estructura creada

una sección de recaudadores una sección forestal y una sección de camineros

y la forestal se mantienen más o menos intacta lógicamente con la evolución de la historia y de las instituciones hoy se ha convertido en la sección de policía de transportes

el transporte tanto de mercancías como de personas y la sección medioambiental que es un orgullo para todos

todos estos días estamos viendo en comisión precisamente qué es lo que pueden hacer las instituciones vascas para luchar contra esa aparente impunidad en muchos casos de los delitos y las infracciones administrativas contra

precisamente por eso viene hoy nuestra preocupación y esta interpelación la podría haber retirado perfectamente si hoy el diputado general de álava cuando le han inquirido en el pleno de control de las juntas generales de álava hubiera respondido claramente a

correcto pero o no ha querido o no ha podido o no sabía y no ha respondido por eso yo vengo preocupado a preguntarle qué es lo que va a ocurrir con esa relación de puestos de trabajo de la ertzaintza en estos momentos tiene cien plazas esas cien creo si no me equivoco y seguro que si me equivoco usted me corregirá

pero la previsión es que hay veinticuatro jubilaciones en el dos mil dieciocho con lo cual quedaría en sesenta y dos o algo más de sesenta y dos ya que me niega con la cabeza sesenta y tantas personas hasta ahora todos hemos sabido y usted y yo hemos hablado de este tema y lo hemos hecho en tribuna y lo hemos hecho en comisión

porque el gobierno de españa había llevado a los tribunales las ope

y no se podía completar toda la plantilla parece que ese escollo ya está resuelto nos lo hemos quitado

que tuvieron en madrid y la plantilla ya va a completarse en el número efectivo el índice o la tasa de falta de efectivos

y comisarías es más o menos de cinco por ciento aquí lo triplica o así nos lo trasladan a nosotros fuentes de los representantes sindicales

en dos mil dieciocho pues estaríamos en cerca de un cuarenta por ciento de esa tasa de plazas no cubiertas

creemos en la importancia de este cuerpo ya no es una cuestión simplemente

que realmente las funciones que lleva a cabo son fundamentales precisamente por el tipo de policía de que se trata yo cuando le veo a usted que habla con pasión del modelo de policía que quiere defender y al que quiere llegar y en el que está trabajando siempre nos habla de una policía cercana de una policía preventiva

lo que da pie aunque sea fuera de sus funciones a que la tasa de delitos de álava sea

españa la presencia de esas personas en el tema que hoy fundamentalmente nos preocupa

el área medioambiental prácticamente ya no patrulla de noche a diario por falta de efectivos es decir ante la falta de efectivos han tenido que reordenar el personal y la patrulla ya no está en la calle

y noche como antes solamente está durante el día y eso lógicamente los malos si me permite utilizar ese término señora consejera lo saben y eso es perjudicial

el medio ambiente alavés eso lo saben los furtivos eso lo saben las empresas que se dedican a hacer vertidos incontrolados en nuestros ríos eso lo saben los que transportan

esta policía medioambiental ese área medioambiental que a usted tanto le gustaría tener en todos los tres territorios y que solamente la tiene en álava hace una labor muy importante de la misma manera que la policía de transportes hace una labor muy importante de todos es sabido que los quinquis del transporte

a burgos de la hora en la que los miñones se iban a comer y en ese momento aprovechaban a cruzar el territorio a toda pastilla con camiones sobrecargados o camiones en malas condiciones la presencia preventiva de los miñones evitaba que esas infracciones se cometieran

lógicamente una forma de evitar accidentes esa área de policía de transporte ya no hace inspecciones a transporte de viajeros porque no tiene efectivos

como yo creo que lo va a hacer pues igual nos evitamos hasta el segundo turno con qué número de efectivos va a completar la relación de puestos de trabajo

en cien personas en cien agentes de la ertzaintza en cien agentes del cuerpo de miñones y cuando lo va a hacer muchas gracias

seguramente nos une esa pasión también por

los miñones y reconozco y coincido con usted que los miñones constituyen un servicio policial consolidado un servicio que en la actualidad está estructurado

cuatro áreas de actividad la de medio ambiente la inspección de transportes por carretera la seguridad institucional

propios de la propia institución de la diputación foral de álava el centro de

áreas que están bien definidas que están establecidas en la ley de policía vasca y que dependen funcionalmente por tanto esas funciones de la diputación foral de álava así pues la sección de miñones depende del diputado general de toda la organización y la definición el desarrollo de esas funciones establecidas por eso señor ruiz de arbulo

en coordinación permanente porque ustedes saben que así como los aspectos funcionales dependen de la diputación foral de álava lo que

corresponde al departamento de seguridad son una parte más de la

la responsabilidad directa del departamento así lo define y así lo establece la ley de policía vasca y así insisto trabajamos coordinadamente para que el servicio

de eficacia de eficiencia policial importante para la ciudadanía alavesa de las últimas acciones de renovación y actualización de los miñones

renovábamos al completo el cien por ciento de la uniformidad una renovación integral largamente solicitada y largamente esperada también por este cuerpo de miñones una uniformidad nueva que responde a la propuesta estética y funcional planteada por la diputación foral de álava y que ha contado con el asesoramiento y con el beneplácito de miñones que conocen muy bien la institución que están muy apegados a la institución y que conocen muy bien también la evolución histórica del propio cuerpo de miñones

de dos renovaciones más por un lado la que afecta a la galonearía de los trajes de gala tradicionales

el grupo de inspección y transporte de carreteras van a contar con materiales que se ajustan a estándares de seguridad y visibilidad más avanzados que el actual

señor ruiz de arbulo preguntarme a estas alturas como lo hacía en la justificación de su interpelación si tengo propósito de

suficientes a la sección de miñones pues creo que solamente puede ser fruto de un interés temporal le recuerdo el dato de que la nueva

pero en total se han destinado más de quinientos mil euros en los dos últimos años a renovación y reposición de distintos

uniformidad y de dotación y no solamente eso no solamente estoy hablando de uniformidad vuelvo a recordarle la sección de miñones depende funcionalmente de la diputación foral de álava que es quien se encarga de organizar y de gestionar los servicios

pero como estructura organizativa depende del departamento de seguridad por eso todo

el programa presupuestario ertzaintza en servicio del departamento de seguridad cubre las necesidades

de exclusiones sin ningún tipo de restricciones respetando siempre al máximo

y en este aspecto diputación foral de álava y el departamento de seguridad vamos de la mano las necesidades técnicas y materiales se corresponden por tanto con las

desde el departamento y tratamos de hacerlo siempre con criterios de eficiencia conjugando y priorizando lo urgente y lo importante así además si en este año dos mil diecisiete la inversión extraordinaria han sido los uniformes también

personales de protección una inversión también importante

importante sustancial también en su protección y así con idénticos criterios de importancia de urgencia y de eficiencia también la renovación del parque móvil que se va a llevar a cabo en el dos mil dieciocho

comisión de hacienda a la hora de presentar los presupuestos o el proyecto de presupuestos que tenemos para el departamento para este ejercicio dos mil dieciocho la licitación de los nuevos vehículos ya está en una tramitación muy avanzada

y en el caso del cuerpo de miñones concretamente furgonetas y todo terrenos pero más allá de estos recursos materiales imprescindibles para la buena ejecución de las tareas

encomendadas recordarle que también se cubren desde el departamento las necesidades de formación de los miñones formación continua necesaria que se imparte en el programa de

miñones como no puede ser de otra manera funciona como cualquier otra unidad

y por ello las necesidades más específicas las necesidades en materias medioambientales en las necesidades en materia de formación

se cubren desde la academia vasca de policía y emergencias donde

millónes de euros en formación para la seguridad pública de euskadi incluidos los miñones sin ningún tipo de exclusión entre enero de dos mil trece

personal de la sección de miñones ha sumado un total de seiscientos sesenta y dos matrículas en diferentes cursos de formación en la academia vasca

hay materias en las que el personal de miñones ejerce también como docente las prácticas de tiro también las realizan en la academia por tanto señor ruiz de arbulo

funcionalmente dependen de la diputación orgánicamente dependen del departamento de seguridad con unas competencias con unas funciones bien determinadas a través de la ley y como le digo bien coordinadas las dos instituciones

que disipe todas esas dudas que ha planteado en cuanto a los propósitos del departamento respecto a la organización y al funcionamiento de miñones y las dudas que

ha dicho y como usted conoce la relación de puestos de trabajo establece que debe haber

y esto tenga claro ni se ha modificado ni se modificará porque no vemos ninguna razón para hacerlo eskerrik asko eskerrik asko

absolutamente todo todo menos lo que yo le he preguntado que es cuándo va a cubrir esos cien puestos de trabajo eso se le ha debido olvidar por favor tome nota y en el último turno a ver si tengo suerte y me responde ha demostrado efectivamente

por la sección de miñones del cuerpo de la ertzaintza por los dos lo compartimos para los dos

consejera a mí me preocupa que esa tasa de no cobertura de los puestos triplique a la de otras secciones desde luego que yo no voy a poner en duda

ni de la organización del cuerpo de miñones mi única duda es cuándo vamos a tener a la patrulla del área de medio ambiente funcionando al doscientos por ciento como lo hacía hasta ahora cuando tenía efectivos cuándo lo vamos a tener en turno de día y en turno de noche cuándo vamos a evitar los problemas que ha habido con la berrea en las estimaciones del gorbea

por esa falta de efectivos que tenían que estar en otras cuestiones y que no tenían miembros suficientes para patrullar todo el tiempo necesario como se había venido

lo sé me lo ha demostrado durante muchos años hace muchos años que nos conocemos y usted siempre me dijo que se iba a completar cuando el gobierno de madrid terminara con los recursos

bien eso ya está asegurado suba usted a la tribuna y díganos por favor cuándo vamos a tener esos cien miñones

según me han dicho a mí de los cien pero lo cierto es que veinticuatro se van a jubilar a partir del uno de enero entonces cuando esos veinticuatro se jubilen desde luego que la patrulla medioambiental desaparece la policía de transportes desaparece igual no funciona ni el que yo no le he citado antes y usted sí

adversidad climatológica como la de hoy es absolutamente fundamental para poder circular por álava señora beltrán de heredia

cuándo vamos a tener cien efectivos en la sección de miñones de
la ertzaintza muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko beltrán de heredia anderea

arbulo ojalá hubiera demostrado este mismo interés que ha manifestado hoy aquí por

probablemente esta pregunta esta interpelación hubiera sobrado seguramente la relación de puestos de trabajo de la sección de miñones está fijada en cien desde el dos mil quince lo conoce bien en la ertzaintza

de la ertzaintza incluidos mikeletes y forales es verdad que usted lo sabe igual que yo a día de hoy ni la

a día de hoy son noventa y dos en el cuerpo de miñones dos personas se van a jubilar efectivamente al acabar el año y

unidad en la que esté completa toda la relación de puestos de trabajo estamos alrededor de un siete por ciento por debajo en todo y casualmente también en la sección de miñones

porque como usted sabe bien estos datos son cambiantes día a día

en función de cómo se vayan produciendo estas bajas pero sobre todo sabe usted tan bien como yo que seguimos teniendo un déficit importante en la ertzaintza y sabe perfectamente cuál es la razón no sé si usted ha venido aquí para que vuelva a recordarle cuál es la razón de ese déficit pero no me va a importar explicárselo nuevamente en este parlamento y que tengan que escucharlo de nuevo estamos así porque el gobierno de españa al gobierno del partido popular

le costó tiempo entender demasiado tiempo como a usted entender que teníamos una imperiosa necesidad de convocar nuevas promociones para cubrir las bajas por jubilación bajas por jubilación

que se estaba produciendo ya en la ertzaintza y que lógicamente también

más de un año de retraso en el proceso de selección de la promoción veintiséis por los recursos que estaban amenazando también el normal desarrollo

yo creo que ahora estamos en buen camino pero es que no tiene que olvidar que desde que convocamos una promoción hasta que los agentes pueden salir a la calle

más de dos años y mire que nos dimos prisa en celebrar los exámenes una vez que se levantó el veto apenas veinte días tardamos en convocar los exámenes de la promoción veintiséis nos dimos prisa pero ni aun así hay que dar tiempo esto es como

a pesar de esas dificultades impuestas por el gobierno de españa el departamento de seguridad

ha sacado tres convocatorias de plazas un total de seiscientos setenta plazas hemos convocado a lo largo de estos años entre el dos mil catorce y el

inmediata en este sentido por tanto ojalá hubiera venido antes a esta preocupación ojalá hubieran tomado también una posición proactiva

estaba liderado y está liderado por el partido popular hubiera levantado el veto para que hubiéramos podido convocar estas promociones y por tanto atender debidamente a la renovación del número

pero no se preocupe estamos en buen camino y no se preocupe también que iremos cubriendo de la mejor manera posible y en la medida de la posibilidades no solamente la unidad o la sección

siempre con el criterio de prestar un servicio de protección de seguridad eficiente y en cuanto a la protección del medio ambiente tengo que recordarle que lógicamente esta no es una misión exclusiva de los miñones

hay un área importante también en la diputación foral de álava que se encarga del cuidado de la protección de la vigilancia y la inspección en todo lo que

el parlamento vasco apoya la reivindicaciones realizadas por diferentes agentes políticos e institucionales

a lo actuado en la comisión de investigación del congreso que hasta ahora han sido negadas

no ha tenido por tanto derecho a la justicia desde el momento en el que el asesinato de su hijo

el derecho de manuel garcía caparrós y su familia a la verdad a la justicia y al reconocimiento